helburuei buruz esa es nuestra pregunta señor consejero dado

y teniendo en cuenta la liquidación provisional cuál es la valoración que usted hace del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria sin más
agradecerle de antemano su respuesta eskerrik asko gorospe

en dos mil diecisiete el gobierno ejecutó el noventa y siete por ciento de los gastos totales una vez exceptuados los correspondientes a la y ferroviaria las amortizaciones de la deuda pública

se cifró en once mil quinientos trece millónes cuatrocientos cincuenta y tres más

debemos destacar la alta ejecución de las partidas correspondientes

el gasto educativo en un noventa y nueve por ciento y los gastos de empleo y políticas sociales en más de un noventa y cinco por ciento gobernuak aurrekontuaren egikaritzea

behar da los recursos adicionales se debieron como sabe y como lo ha comentado a un momento de los ingresos concertados por encima de lo presupuestado

diario excepcional alcanzado en relación a las liquidaciones de cupo del periodo dos mil siete dos mil dieciséis

y teniendo en cuenta también los acuerdos de cupo las cuentas vascas presentan un superávit

doscientos noventa y cinco millónes de euros este superávit es real sí es comparable con que el año dieciséis o con el que se va a producir el año dieciocho pues no porque hay que homogeneizarlo si los homogeneizáramos

cinco décimas por debajo del que se produjo el año anterior y cinco décimas por debajo del límite que teníamos para este año con lo cual también hemos cumplido estos objetivos con una holgura y por otra parte está una cifra del déficit que dio el estado del uno coma cinco por ciento del pib que yo creo que es mejor olvidarse porque corresponde estrictamente a una cuestión

helduko gara hemos escuchado a distintas voces

que los excedentes del dos mil diecisiete se emplearan para financiar gastos del presente ejercicio sobre todo en esta parte de la bancada no es posible no es legal hoy los superávit presupuestarios hay que aplicarlos

en el que se producen y reducir la deuda pública y así lo hemos hecho en más de una ocasión qué más nos hubiera gustado a nosotros que poder

quizás en un futuro tal y como está planteado en el proyecto de presupuestos actual

aplicar a inversiones singulares y no recurrentes del ejercicio siguiente

definitiva tal y como pretendíamos hemos cumplido con los requisitos de déficit público y ejecutado nuestros compromisos

es retroceder porque nos van hacer retroceder desde mi punto de vista

beno señor urkullu la verdad es que no se cortan

el inicio de pacto con coalición canaria para las elecciones europeas les pone otra vez con alguien que apoya el ciento cincuenta y cinco y van a ir entonces

un gobierno o a disolver un parlamento el movimiento se demuestra andando y ustedes hacen

de volver a pactar con el partido popular eta berriz ere partidu popularrarekin desiatzeko nolabaiteko

aun cuando a usted no le sirva de nada que yo en mis respuestas a sus preguntas en las que me mezcla como responsable del partido nacionalista vasco

por mucho que usted no quiera entenderlo en todo caso galdera da ia uste dudan eskuduntza mugatuak dituen egungo

no sé qué tiene que ver lo del ciento cincuenta y cinco lo de la coalición del pnv con canarias para las elecciones al parlamento europeo con lo que es la sustancia de la pregunta

eguneratzea nuestro programa aboga por ampliar el horizonte del autogobierno con el fin de ir conformando en euskadi un espacio social propio y diferenciado

arbitrando mecanismos institucionales más eficaces para la defensa del autogobierno vasco seis tal y como ayer aprobó este parlamento

lehendakari jauna en el marco de las negociaciones que se están produciendo entre las formaciones políticas de cara a los presupuestos generales del estado en el año dos mil dieciocho

con recurrir las cuentas del gobierno vasco por el incremento salarial del funcionariado se lleve o no se lleve a cabo señor urkullu cree que sus pactos con el partido popular son buenos para euskadi

alcanzado por el gobierno vasco con el gobierno español han sido

hace tres semanas ya se lo dije su afición y la de su gobierno por

ustedes se ponen medallas a sí mismos se dan la razón ustedes solos se felicitan

para el país reconocer que esos pactos no están resultando en lo que ustedes esperaban parece que no entra en sus planes

hoy a seguir sacando pecho de estos pactos todavía el partido nacionalista vasco su partido con sus pactos han creado un monstruo

en su socio preferente y hoy sus juegos con fuego

a todas queman a los pensionistas vascos queman a las mujeres vascas queman a los funcionarios vascos y al profesorado de la educación pública y de verdad todavía

que están siendo un fiasco yo creo que

señor lehendakari que quizás ustedes actuaban pensando que era lo mejor para este país pero que la realidad a día de hoy es que esos pactos no son buenos para la ciudadanía vasca no son buenos para euskadi yo creo que hoy toca reconocerlo señor urkullu reconózcalo porque no pasa nada que esto es un secreto a voces que esto lo sabe todo euskadi ya hoy

en cualquier calle de euskadi le dirán que no entienden ni comparten los pactos con el partido popular

cuando negaban cualquier pacto con el partido popular a esas otras declaraciones suyas señor urkullu en las que se vino usted arriba diciendo que

a los presupuestos españa estaría como irlanda eso dijo usted o que los pactos con el partido popular refuerzan el autogobierno vasco hoy

o preferiría ser un poquito más prudente porque estas semanas el partido popular les ha dejado en evidencia a ustedes

los presupuestos de su gobierno ese mismo presupuesto que pactaron con ellos mismos lehendakari jauna hay un refrán

y eso es lo que les está pasando a ustedes a su gobierno

con el partido popular tienen el monstruo fuera de control tienen al monstruo

amenazando con hacer trizas nuestro autogobierno tienen al monstruo despechado por sus juegos políticos

visto el panorama que se está presentando en el estado con el partido popular

por ver quién es más centralista se necesitan menos juegos políticos y más ética ética para no sostener un gobierno corrupto como el de mariano rajoy ética

para no pactar con quien pisotea la dignidad de nuestros pensionistas y le digo más

ayer se han retratado con la cuestión de las pensiones su partido y los presupuestos

isiltasuna mesedez señor martínez creo que
si algo no me falla en la memoria pero en todo caso

me la recuerde agradecería que me recordara cuando he dicho yo lo de irlanda que ha dicho en relación a los presupuestos si es que lo he dicho yo

en todo caso le digo que los pactos alcanzados por el gobierno vasco con el gobierno español han sido buenos y positivos para euskadi las inversiones en la alta velocidad son positivas los acuerdos para la llegada soterrada del tren a las capitales también

son positivos los acuerdos alcanzados en la junta de seguridad para la renovación generacional

los acuerdos alcanzados para subvencionar iniciativas y asociaciones culturales o académicas en euskadi también son positivos

son buenos para euskadi no sé cuál de estos pactos o acuerdos considera usted que resulta negativo para los intereses vascos es cierto que el gobierno español ha amenazado con recurrir nuestros presupuestos aprobados por cierto con el voto favorable

y el gobierno vasco va a defender la posición y mantener un incremento retributivo que ha sido ya pactado en la mesa de la función pública espero desde luego contar con el respaldo

el mismo que obtuvimos por ejemplo con el respaldo de su grupo en el congreso de los diputados al acuerdo alcanzado con el gobierno español en relación con el concierto económico y el cupo

que en materia de función pública el proyecto de presupuestos generales del estado pueda tener una técnico intervencionista y reglamentista que

competencias autonómicas y con riesgo esta vez de una vuelta de tuerca y es que se quieran someter a la autorización previa del ministerio de hacienda todas las contrataciones y nombramientos de personal temporal e interino

agilidad y en la capacidad de gestión del personal empleado público

y me preocupa también en la medida en que valoro muy negativamente ese recurso del gobierno español a nuestros presupuestos pero la amenaza de este recurso

beraz alternatiba izatea eta gauzatu egin ahal izatea nuestra alternativa sin embargo es seguir defendiendo los intereses de euskadi propiciar acuerdos

para el empleo para los servicios públicos el concierto económico y el autogobierno y por cierto hago mía el acuerdo del uno de marzo eskerrik asko lehendakari jauna

gracias señora presidenta lehendakari consejeros consejeras señorías buenos días a todos y a todas señora san josé la negociación colectiva es una herramienta clave la más importante diría yo para avanzar en la mejora de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras además es un instrumento eficaz

es a los agentes sociales a quienes incumbe de manera directa su desarrollo

tanto el ejecutivo como el legislativo podemos adoptar medidas para impulsar los acuerdos de parte por eso desde todos los ámbitos se saludó con sumo agrado el acuerdo interprofesional

en el ámbito de la comunidad autónoma del país vasco firmado el diecisiete de enero del dos mil diecisiete este acuerdo venía a dar continuidad y mayor amplitud al conseguido

el acuerdo interprofesional se firmó al amparo del estatuto de los trabajadores poniendo como referencia los artículos ochenta y tres y ochenta y cuatro del mismo

territoriales interterritoriales suscritos en euskadi sobre cualquier convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal persistente o posterior

que los ya contenidos en el también citado acuerdo de la mesa de diálogo social como son la protección del ámbito vasco de la negociación y la búsqueda permanente de acuerdos el grupo socialista hizo una valoración altamente positiva del acuerdo

contra este positivo acuerdo la federación española de asociaciones dedicadas a la restauración social interpuso

ante la sala de lo social del tribunal superior de justicia del país vasco dicha demanda fue registrada el cinco de marzo y admitida

veinte del mismo mes el tribunal ha citado a las partes el próximo día

reitero nuestra defensa del acuerdo y nuestro deseo de que siga vigente el grupo socialista considera

es fundamental el acuerdo entre partes y los agentes sociales de euskadi han demostrado esa voluntad que nosotros apoyamos plenamente sin perjuicio del derecho que asiste a quienes se consideren negativamente afectados por el acuerdo y del respeto que mantenemos ante la resolución de los tribunales consideramos que el asunto merece una valoración política señora san josé consejera de trabajo y justicia

al acuerdo interprofesional realizado por la organización empresarial

lehendakari sailburuok legebiltzarkideak egun on guztioi efectivamente señoría el pasado cinco de marzo hemos tenido conocimiento de que en el tribunal superior de justicia del país vasco en la sala de lo social

el acuerdo interprofesional en relación con la estructura de la negociación colectiva en el ámbito de la comunidad autónoma del país vasco acuerdo interprofesional alcanzado

el pasado diecisiete de enero y que publicamos en el boletín oficial del país vasco del tres de marzo como bien ha dicho usted este acuerdo fue recibido con satisfacción por todos los sectores de la sociedad vasca que pudieran verse afectados por prácticamente todas las fuerzas políticas

por el conjunto del gobierno vasco y particularmente por el departamento de trabajo y justicia que en cumplimiento de la legalidad

y quiero resaltar este matiz de legalidad del acuerdo que hizo que lo publicáramos nuestra valoración positiva se basaba también hay que decirlo que

negociación que estaba estancada nos encontramos hoy ante la impugnación del acuerdo por parte de la federación española de asociaciones dedicadas a la restauración social y nos parece que la pretensión

estatal no es de recibo la defensa de un convenio concreto no puede impedir que las organizaciones sindicales más representativas junto a la patronal vasca

la negociación colectiva en su ámbito de actuación tal y como se explicita en el acuerdo alcanzado y que ahora pretenden anular estoy convencida de que lo saben mi segundo mensaje la federación española de asociaciones dedicadas a la restauración social debe reflexionar sobre el alcance de su iniciativa y retirar su demanda así se lo pido desde esta tribuna parlamentaria

firmeza y rotundidad debe retirar esa demanda la lectura literal del acuerdo alcanzado en euskadi nos indica que el mismo se alcanzó

y establecía con claridad la prioridad aplicativa de los convenios y acuerdos territoriales que se suscribiesen en euskadi pero también se referenciaban las materias reservadas al ámbito estatal en el artículo ochenta y cuatro punto cuatro del propio estatuto por ello

durante los próximos días veremos cómo transcurren los hechos al gobierno vasco y concretamente al departamento de justicia y trabajo nos hubiera gustado personarnos en los juzgados

espero que a la defensa de los firmantes se una el criterio de los demandantes

el asunto pueda resolverse en el acto de conciliación sin llegar al pronunciamiento judicial por último también quiero hacer una mención expresa en defensa del acuerdo interprofesional alcanzado y me dirijo directamente a los firmantes ela lab comisiones obreras ugt y confebask

negocien y acuerden convenios sectoriales en euskadi esta es la mejor defensa del acuerdo que sea válido para miles de trabajadores y trabajadoras que no tienen convenio en euskadi

háganlo posible no está en nuestras manos y sí en las suyas eskerrik asko eskerrik asko sailburu andrea

señoras y señores consejeros egun on guztioi

porque tengo que confesarle que el pasado veintisiete de marzo tras el consejo de gobierno usted hizo unas declaraciones una comparecencia que

con usted la misma mire ese veintisiete de marzo en su comparecencia usted

como enésima agresión al autogobierno algo que está en el adn del partido popular como una amenaza al entendimiento

de un procedimiento para corregir lo que no es más que una disfunción técnica consistente en el hecho de que unos presupuestos de una comunidad autónoma contemplen como es el caso un incremento en la subida salarial a los funcionarios

esto inicia un procedimiento que usted califica como lo acabo de recordar la sorpresa y le confieso que nos ocupó mucho tiempo

anunciaba o encendía la sorpresa viene porque el seis de noviembre del año pasado vamos a hacer un poco de historia usted ya dijo que erkoreka aclara que el incremento salarial del uno coma cinco a funcionarios será efectivo

cuando una normativa básica lo autorice es decir desde noviembre del año pasado su gobierno y usted concretamente ya era conocedor de que para que esta medida no tuviera ningún problema de carácter técnico tenía que estar aprobado en los presupuestos generales del estado

cuando el gobierno de españa como ya es público y notorio ha llegado a un acuerdo con los sindicatos de la función pública para incrementar el salario de los funcionarios en el conjunto de españa

algo más de lo que hemos acordado también en euskadi es decir no hay una discrepancia material en el fondo de lo planteado la sorpresa continúa estamos justificando ese tiempo que le dedicamos a intentar analizar lo que usted porque el veintiuno de marzo usted firmó con la vicepresidenta del gobierno la constitución de una comisión bilateral de cooperación para resolver esta cuestión de carácter técnico el veintiuno de marzo la sorpresa continuaba cuando hay otras ocho comunidades autónomas en el conjunto de españa nada más y nada menos que ocho más tres de ellas gobernadas por el partido popular que están en unas circunstancias exactamente iguales idénticas

por lo tanto señor erkoreka es existe de verdad hoy tanto tiempo después puede usted seguir afirmando que existe una lacerante agresión al autogobierno por la puesta en marcha de un procedimiento exclusivamente técnico para resolver un problema que no es más que un problema de habilitación legal como el descrito muchas gracias

en el que se identifican hasta diez eventuales incumplimientos de la constitución no es una invitación a pasarnos

sobre cuestiones jurídico constitucionales entre tapa y tapa no no

en la ley orgánica del tribunal constitucional concretamente en el apartado relativo al plazo para la interposición del recurso de inconstitucionalidad por tanto el mecanismo previsto en ley para la puesta en marcha del recurso de inconstitucionalidad en marcha este es el primer trámite de hecho le puedo decir que la práctica totalidad de las sentencias que el tribunal constitucional ha venido dictando en los últimos años

han arrancado con un procedimiento que usted califica de técnico irrelevante pero que empiezan ahí empiezan ahí estamos en el ámbito que la ley dedique a la regulación del recurso de inconstitucionalidad el primer trámite y cuál es el pecado en el que incurre el parlamento vasco cuando aprueba una ley de presupuestos que ahora quiere llevar al tribunal constitucional el gobierno central

que acuerdan un incremento retributivo para los empleados y empleadas del sector público autonómico vasco que es idéntico

con sus sindicatos y en segundo lugar incorporado al proyecto de ley de presupuestos del gobierno remitido a la cámara del gobierno central remitido a la cámara bueno entonces cuál es el problema de fondo

por qué se empeña el gobierno central en plantear esta cuestión ante el tribunal constitucional qué es lo que persigue que el gobierno vasco

haciendo un reconocimiento de sometimiento absoluto a las normas básicas del estado usted comprenderá que en estas circunstancias es que claro que se trata de una agresión

que entraña una agresión al autogobierno vasco y además gratuita e inexplicable en este caso porque efectivamente el incremento retributivo previsto aquí por el parlamento vasco

por qué se pretende esto qué se quiere una sumisión un acto de sumisión y de humillación por parte del gobierno vasco

lo que yo tengo que decirles que el seis de noviembre usted advierte de que lo aprobado lo contemplado en los presupuestos de la comunidad autónoma necesita la habilitación de los presupuestos generales del estado

un procedimiento que se pone en marcha independientemente de las voluntades políticas de los gobiernos y es que cuando una norma en este caso un presupuesto de una comunidad autónoma le digo que hay ocho más

se pone ese procedimiento en marcha pero es que usted acuerda con la vicepresidenta usted acuerda resolver esto en la comisión bilateral con naturalidad y con normalidad estamos en un buen tiempo señor erkoreka de verdad yo entiendo que salir los martes para

a alertar de cosas que suceden dramáticas que vienen los monstruos como diría el señor

en la que más claramente se pone de manifiesto que la acción coordinada entre legislador básico del estado y el tribunal constitucional vacía literalmente

estamos hablando del ámbito de la función pública en el que fíjese hace unos años el gobierno vasco acordaba con sus sindicatos si podía tomar decisiones relevantes en prácticamente todo lo que tenía que ver con el empleo público

las jornadas laborales licencias permisos empleo público ope y demás ahora todo eso solo lo puede decidir después de que montoro se haya pronunciado al respecto y lo haya negociado con su sindicato así que el marco normativo el marco competencial

si estamos en un terreno en el que conviene alertar o no sobre las nuevas vueltas de tuerca que se contemplan

a una disposición que han incorporado ustedes al proyecto de ley de presupuestos que han remitido al congreso de los diputados gravísima como se haga efectiva la amenaza de que toda contratación toda contratación temporal en la administración pública todo

es que estamos sometiendo a la actuación de las administraciones públicas y a las gestiones del personal

permíteme señor sémper antes he salido antes porque me parecía que su pregunta era irrelevante es una broma

pero desde luego la respuesta del señor erkoreka de los hachazos al autogobierno ha merecido la pena

pero desgraciadamente también es algo de lo más habitual pero volviendo porque este es el inicio

y además se referían a los barómetros de empleabilidad y empleo público universitarios en la edición de máster

por lo menos porque algunos los han llevado desgraciadamente por un lodazal pero sí vamos a recordar porque a mí me molesta mucha

han hecho porque se quieren apropiar del trabajo ajeno para mejorar la imagen propia pero la realidad es que los profesionales que tienen un máster se han formado durante más de veinte años han sido evaluados en numerosas ocasiones han realizado prácticas

con todo ese bagaje en sus espaldas no llegan a mileuristas el cuarenta y tres coma dieciocho están por debajo de mil doscientos euros y dos tercios de ellos

desde luego el sueldo no es el único indicador de la precariedad pero también cuando vemos son más los contratos temporales

en las mujeres que en los hombres también ocurre en los salarios los sueldos de los hombres menores a mil doscientos es en el treinta y cinco por ciento de los casos pero en el caso de las mujeres

la combinación desde luego de sueldos temporalidad y tipos de jornada son los indicadores de la precariedad

ea zenbat dagokien y se está creando una realidad en la que el mercado laboral juvenil enfrenta la incertidumbre y la precariedad todos los días enlazando

contrato mal pagado tras contrato mal pagado y muchas veces también a tiempo contractual parcial

el sueldo mínimo que el gobierno vasco da por bueno en el programa lehen aukera es un treinta y dos por ciento más bajo bastante más bajo que la media que la media de los recién graduados y eso no es tirar el mercado para arriba sino para abajo señor

y sin embargo este no es empleo de calidad y la verdad es que le decía al principio creemos que nos va a agradecer hacerle la pregunta porque la pregunta la planteamos también como una oportunidad

y también para la posibilidad de alcanzar acuerdos amplios si apostamos entre todos por la dignificación del empleo horregatik gaur lehendakariari galdetu nahi dioguna hori da

le voy a responder yo porque entendemos que las preguntas que usted le realiza al lehendakari puede que yo tenga más información y le de datos más precisos para avanzar en ese camino que ustedes nos proponen y además que creo que compartimos todos no solamente en el ámbito de la reducción de la tasa de desempleo que es un objetivo

pero también en el ámbito de la calidad del empleo tanto en lo que es la remuneración como la

la crisis la ha golpeado duramente al igual que a toda nuestra sociedad y a todos nuestros tejidos tanto el productivo como el económico zorionez

finalizar su proceso formativo la tendencia a la reducción de las tasas de paro juvenil en euskadi es positiva disminuye desde el año dos mil catorce y si sitúa en estos momentos en el última trimestres del dos mil diecisiete en el quince coma uno por ciento

ya estamos trabajando para que la juventud se inicie en el empleo

su emancipación y su proyecto de vida además insistimos en la necesidad de que instituciones empresas y sociedad trabajen y colaboren

por tanto la precariedad laboral que viven los jóvenes vascos nos preocupa mucho

desde el gobierno vasco creemos que siendo el empleo la base de un tejido relacional básico y fundamental para el desarrollo de las personas

a través del trabajo se debe favorecer la potenciación de las cualidades de la persona lo que a su vez revierte en el positivo desarrollo

todos vamos a salir beneficiados hori dela eta

pertsona guztientzat baina bereziki gazteentzat el modelo laboral de nuestro entorno no ha sido históricamente el más propicio para la juventud especialmente en situaciones de crisis

no ha sabido conjugar el incentivo y la protección de la experiencia con el incentivo a la innovación que representa las personas trabajadoras jóvenes pero ahora estamos transformando ese concepto entendemos trasnochado si se retrasa la edad de acceso al empleo o la vivienda se ralentiza el inicio de un proyecto de vida independiente

se retrasa la aportación al esfuerzo común al sistema de pensiones y además aumenta el envejecimiento de la población los datos de paro y ocupación no son una fría estadística ya que afecta a la economía a la salud a la dignidad de las personas y reflejan el vacío y la pérdida de sentido para quienes involuntariamente habitan en esa situación

creemos firmemente que para el mantenimiento de una sociedad cohesionada es necesario el crecimiento económico venga acompañado de un crecimiento social sostenible

uztatzen ditugu consciente de esta realidad

de los mínimos salarios que los jóvenes cobran en sus primeras experiencias laborales y que en algunas ocasiones se prolongan demasiado en el tiempo y siendo conscientes de esta realidad

respecto al empleo en ese plan se definen cinco objetivos estratégicos dieciocho líneas de actuación y cuarenta y dos iniciativas prioritarias los cinco objetivos prioritarios para mejorar la situación del empleo son

segundo más jóvenes con empleo de calidad para ellos se facilitan las primeras experiencias laborales de la juventud

y se trabaja para mejorar las oportunidades de empleo de las personas de este colectivo en tercer lugar mejorar las condiciones laborales de la juventud incidiendo en la información y la comunicación

más personas jóvenes emprendedoras gracias al impulso del emprendimiento y cinco inclusión laboral de jóvenes en riesgo de exclusión uno de los pilares para evitar la exclusión juvenil

y que se puso en marcha en el año dos mil catorce que se dirige a la contratación de personas jóvenes menores de treinta años con formación profesional o universitaria en situación de desempleo

se exige por tanto que el empleo se ha encajado y una experiencia laboral significativa para las personas lehen aukera no es un programa de becas sino un recurso cuyo objetivo principal es potenciar la empleabilidad de los jóvenes ofreciéndoles una primera oportunidad laboral mediante la contratación

pero al mismo tiempo los jóvenes no encuentran trabajo porque se les exige una experiencia previa sin que nadie les dé una oportunidad ekimen horri esker

izatea el salario que establece la convocatoria es un requisito mínimo señora larrion ni en ningún caso limitativo del establecimiento y percepción salarial de cuantías superiores

no inferior al setenta por ciento de la jornada laboral por tanto

para que nuestros jóvenes accedan al mercado laboral en condiciones que les permitan iniciar una carrera profesional que siendo conscientes

señalo en este aspecto que el ochenta y nueve coma setenta y nueve por ciento de los contratos subvencionados en la última convocatoria ha superado

además también impulsamos iniciativas como son el contrato relevo abierto a todo tipo de perfiles formativos que supone también una fuente generadora de empleo tanto a nivel de las empresas como de la administración pública así en contrato relevo se incentiva la renovación de las plantillas empresariales

y retención del conocimiento y de la experiencia interna adquirida por las personas relevadas

que son contratadas mediante un contrato relevo a jornada completa

cuando se jubile totalmente la persona relevada insisto conseguir que la juventud vasca cuente con los mejores medios para su formación

de las empresas de las instituciones y de toda la sociedad nosotros como institución estamos poniendo en marcha una serie de medidas de apoyo como las que le he comentado que favorezcan

vamos a seguir trabajando en los planes y programas que tenemos en marcha y que ya están dando sus frutos como claramente lo reflejan los datos favoreciendo una mejor situación para nuestra juventud

para ello el programa lehen aukera es una herramienta fundamental facilitando el acceso a una primera experiencia laboral mediante un contrato de trabajo

inicial temporal que les permite iniciar su carrera profesional todo ello con la necesaria implicación de todos de las empresas de las instituciones y de la propia sociedad

es una de las más progresistas de europa y cuenta con recursos económicos siempre limitados pero proporcionalmente más elevados al contexto de otros países de la unión

todo lo contrario y tenemos que seguir trabajando especialmente en este tema para conseguir que nuestra juventud cuente con los mejores medios para su formación y acceda a un mercado
y a un trabajo digno eskerrik asko

pero esa es la cuestión que para ustedes les parece que lo mínimo admisible dónde lo colocan esa es precisamente la cuestión solo faltaría que se penalizara lo que está por encima de eso pero les parece lógico que ese sea el techo a partir del cual

nadie ha hablado de eso significa de para ustedes cuál es el mensaje político de qué les parece admisible para la contratación de jóvenes me dice que efectivamente tal y como establece el programa lehen aukera les parece admisible un sueldo neto por debajo de mil euros para los graduados y un sueldo también bruto

conocerá usted sino se lo paso pero seguro que lo conocerá el informe eurofound de dos mil diecisiete sobre contrataciones fraudulentas donde precisamente se recoge que en el estado español y en esto no tenemos ninguna diferencia

que los trabajadores inexpertos no son productivos para justificar precisamente que es necesaria esa formación para justificar precisamente la precariedad que se ofrece

no es porque sea la norma en europa todo lo contrario una vez que uno va a europa

y es muy diferente al tratamiento que ofrece el estado español y desde luego lehen aukera entre ellos también porque en eso no hay una grave diferencia

pero desde luego no es el único que establece así si usted también

europeo de empleo de dos mil diecisiete donde precisamente también se utiliza la metodología establecida por el premio nobel de economía

en detrimento de la calidad de trabajo y la respuesta de dos mil diecisiete

de los puestos de trabajo de remuneración intermedia y un sólido incremento de los puestos de trabajo de remuneración baja y decisiones desde un gobierno de cuál es el techo mínimo desde luego influyen en si vamos a consolidar los tramos de remuneración intermedia si vamos a empujar

que se consoliden los incrementos de los puestos de trabajo de remuneración baja esas son el tipo de decisiones políticas sobre las que un gobierno puede actuar confebask

orientar a los jóvenes a profesiones con los mejores salarios y mencionaba

vamos a ver los datos que tiene usted en lanbide para esos titulados porque sabe cuáles son los datos de personas que han tenido que emigrar por razones de trabajo en esa promoción

hemos perdido un veinticinco por ciento de la promoción en arquitectura trece por ciento a otro país

en ingeniería automática el diecinueve por ciento a otro país el diez por ciento a otra comunidad el veintinueve por ciento de la promoción

otra comunidad autónoma medicina otro de los que apunta confebask veintiocho por ciento a otra comunidad autónoma y ade

ocho por ciento a otra comunidad autónoma cuál es el mensaje que se les está

cuál es el mensaje que les está dando también lehen aukera porque las condiciones del programa lehen aukera para una persona con titulación universitaria son más bajas que el sueldo mínimo de cualquier trabajador de inglaterra escocia o gales que está en mil cuatrocientos sesenta y dos

de bélgica que está en mil quinientos sesenta de los países bajos que están en mil quinientos setenta y ocho

cómo no van a emigrar cómo no van a emigrar desde luego parte de esa promoción cuando el mensaje que se les da

son más altos si el compromiso que tenemos como país no es fomentar esa subida esa es la cuestión que les planteábamos hoy aquí hay que plantearse qué actuar como país

con mensajes que desde luego deberían de ser muy alejados de que los recién licenciados no son productivos

acumuladas suficiente para ser unos valores para esta sociedad

las desigualdades sociales les toca a ustedes actuar y esa era la pregunta y esa es la que les hacemos ahora permitirán que sigan este tipo de situaciones escandalosas y las avalarán

señora larrion yo creo que usted y yo y todos los que estamos aquí presentes compartimos la preocupación por que las personas sobre todo los jóvenes

tengan unos empleos de calidad que les permita llevar adelante un proyecto de vida

cuáles eran las cuestiones que teníamos que abordar y la situación en la que los jóvenes universitarios pero no solamente los universitarios en general todos los jóvenes que trabajan en este país tienen las mismas dificultades tanto de temporalidad como de salarios y por tanto nosotros no solo nos centramos

o de los postgrados sino también en la gente que tiene otras cualificaciones

desde el ámbito de la universidad también tendrá que hacer una reflexión y en ello lo están haciendo

y de alguna forma formen los profesionales que las empresas están realizando y para eso desde el departamento de educación junto con la universidad y la rectora están realizando ese trabajo de análisis para en lo que es los profesionales que las empresas en el futuro van a realizar y van a necesitar además nosotros como gobierno sí que estamos haciendo cosas

las hemos ido plasmando en diferentes acuerdos como el que pasado junio en el año dos mil diecisiete firmamos junto con las universidades con el objetivo

oportunidades que los jóvenes en este caso sí que eran universitarios tendrían de cara a tener esos empleos dignos o con unas condiciones laborales adecuadas pero el programa lehen aukera en el que se ha centrado tiene como objetivo principal

una oportunidad inicial a los jóvenes que en este momento no la tienen cuando usted me citaba los salarios que los jóvenes en otros países europeos alemania noruega lo ha estado usted comentando tenían las cuantías económicas de mil cuatrocientos euros la nuestra es mil doscientos ochenta y cinco para los licenciados superiores

sinceramente señora larrion creo que son bastante proporcionales a lo que estos países europeos que ustedes ponen como ejemplo

yo sí que quisiera poner en valor el programa lehen aukera en el sentido de que

a las personas jóvenes para que trabajen en algo relacionado con lo que han estudiado en un momento y en una etapa temporal inicial de su carrera profesional que les permita romper como le decía anteriormente ese círculo vicioso

que inicien esa experiencia profesional que les permita temporalmente con esos salarios que entendemos que son suficientes para iniciar esta experiencia profesional inicial una carrera profesional que les permita

de su formación y de su trabajo sus salarios porque los jóvenes tienen formación y son los jóvenes los que mayor formación tienen de los últimos tiempos lo que les falta es experiencia

que los empresarios también necesitan a la hora de llevar acabo las contrataciones y lo que nosotros les estamos ofreciendo es dado que tú tienes esa formación vamos a complementar

de experiencia con este programa lehen aukera con un contrato

en la mayor parte de los casos casi el noventa por ciento de los contratos que se han firmado eran a jornada completa y con un salario que es temporal que lo que sí sería un error es que ese salario se fuera cronificando en el tiempo y se fuera prolongando más de lo mínimamente necesario yo sí que quisiera terminar diciéndole señora larrion que la tasa de empleo de paro juvenil en euskadi ha ido bajando progresivamente desde el año dos mil catorce

algo tendrán que ver también las cosas que desde el gobierno estamos poniendo en marcha también la perspectiva de los jóvenes es que van a tener un futuro más adecuado el setenta y ocho por ciento confía en encontrar empleo en un plazo de tiempo inferior a un año

solamente nosotros lo estamos trabajando con las universidades lo estamos trabajando con los empresarios

eztabaidaren erdigunera gako batzuk ekarri ditu eta horri heldu nahiko nioke jarraian estamos de acuerdo en la necesidad de contar con herramientas de planificación estratégica en materia de igualdad como son estos planes de igualdad pero tenemos la sensación

estos planes de igualdad se han convertido más en el objetivo que en

es decir que necesitamos planes para poner en marcha políticas reales con presupuestos específicos y con evaluaciones periódicas para evaluar el impacto y los resultados

y que se queden en los armarios de algunos ayuntamientos o empresas

eman behar horretan uste dut hausnarketa bat mahai gainean jartzea garrantzitsua dela el gasto realizado en recursos y el tiempo que el personal técnico tiene que invertir

se corresponde con atender a un mandato concreto de la ley el de la obligatoriedad de redactar y aprobar un nuevo plan de igualdad cada legislatura

eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzeko esta red bai sarea señora etxebarrieta y usted lo sabe bien es un buen ejemplo de un proyecto específico que nace de impulso del plan para la igualdad entre mujeres y hombres

en toda la administración pública y en la sociedad vasca en general

y no objetivos concretos no es su función ni la ha sido nunca el nuevo plan que se encuentra en preparación es el séptimo con que cuenta nuestra comunidad como también usted lo ha indicado una comunidad que insisto que es pionera en igualdad como lo demuestra la puesta en marcha de emakunde

o la propia puesta en marcha de los planes de igualdad y en todo este recorrido integral ha quedado archidemostrado que la participación de los agentes económicos y sociales ha sido

mire respetamos y tomamos en consideración las propuestas planteadas por el consejo económico y social

no le corresponde comprometer un contenido económico este plan establece las prioridades acordadas propone una estrategia global y a continuación

y recursos que como usted bien ha dicho puede ser en recursos personales o en recursos económicos también cuestionable lo que puede suponer también la aplicación de este plan en cada una de las instituciones pero es una cuestión que afecta a las propias instituciones en su caso

planes evaluados como usted bien conoce también y mejorados en cada ocasión

planes ejecutados con un alto grado de compromiso quiero reiterar también que nuestro compromiso es también

que las instituciones vascas están comprometidas con la igualdad y que también las empresas de forma creciente la sociedad vasca yo creo que sigue avanzando en igualdad que hemos recorrido un camino que queda mucho por hacer sí evidentemente y lo vengo reconociendo sin ninguna duda ahora bien convendrá también conmigo señora etxebarrieta en que la sociedad vasca

y que su compromiso ha sido creciente a mí personalmente nada me hace sospechar que esto no vaya a seguir siendo así desde luego el compromiso del gobierno en su conjunto

está garantizado porque en nuestro programa la igualdad tiene la consideración de objetivo prioritario de país beraz

nuevos cauces para seguir avanzando y mejorando incluso fomentando e incrementando la implicación de la propia estructura administrativa

del propio gobierno vasco el nuevo plan contempla la dimensión de la coeducación como le he manifestado anteriormente el nuevo plan responde al objetivo de promover la transformación económica y social el gobierno vasco está elaborando un plan específico por ejemplo para erradicar la discriminación salarial y reducir la brecha salarial de género y lo hemos puesto en marcha con la participación de los agentes económicos y sociales

no todo es presupuesto propio del gobierno vasco sino también todas las acciones que incita a acometer el propio gobierno vasco en el conjunto de la sociedad ya sea en la colaboración público institucional o ya sea en la colaboración público privada

áreas de mejora por ejemplo también en el ámbito de la violencia contra las mujeres zeharlerrotasuna planteatu egin duzu

las hemos elaborado todas las que he mencionado en mi primera intervención como también las que estamos queriendo impulsar

porque insisto que la igualdad es una prioridad en euskadi lo es de forma creciente desde la puesta en marcha de emakunde desde la aprobación de la ley de igualdad desde la aprobación del primero plan

creo sinceramente que euskadi ha demostrado un compromiso colectivo con la igualdad y que lo va a seguir demostrando y que ese es nuestro compromiso

en cuanto a lo que es también la participación y la apertura la participación usted conoce señora etxebarrieta cómo es posible que desde el consejo de dirección de emakunde también

en el consejo de dirección de emakunde se facilite esa participación y lo sabe perfectamente señora etxebarrieta beraz berdintasunean aurrera egitea lehentasun bat da guretzako

señora etxebarrieta yo sí creo que en cuatro minutos es posible recoger lo que usted ha dicho

y concretamente manifestó que es preciso hacerla más atractiva para favorecer la incorporación de la mujer porque no se puede prescindir del talento del cincuenta por ciento de la sociedad y añadió necesitamos que la mujer se incorpore más en la industria creo que es posible en cuatro minutos recoger también estas menciones además de la que usted ha hecho

me consta señora etxebarrieta el compromiso empresarial con la formación dual tanto en la formación profesional como en la universidad de hecho confebask es una de las organizaciones que recibirán este próximo lunes un premio de la asociación por su compromiso en favor de la formación profesional y la inserción de alumnos y alumnas en las empresas y este camino permite avanzar en la reducción de la brecha salarial

el compromiso de las organizaciones empresariales con ese objetivo por el que debemos seguir trabajando sin descanso eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako

legebiltzarkideok señor lehendakari en dos mil dieciséis gamesa era la principal empresa vasca en el sector de las energías renovables era nuestra joya de la corona diez mil proveedores en el mundo de los cuales ochocientos están estaban en euskadi

sin embargo gamesa tenía un problema y es que sus principales competidores vendían más del cincuenta por ciento de los molinos de los aerogeneradores en el sitio donde estaban radicadas mientras que gamesa

no solo en euskadi sino en toda españa gracias a las reformas del sector energético propiciadas por el partido popular por el partido socialista y de las que su partido fue cómplice también eso llevo a que en dos mil diecisiete en abril de dos mil diecisiete

de la empresa por parte de los accionistas vascos en este caso iberdrola que pasaron a ser minoritarios

apenas un año después ni siquiera ha hecho un año desde la absorción ya ha denunciado que hay un riesgo serio

tanto de mantener la sede social en euskadi como el centro de decisión en españa sin embargo la actitud la postura pública de su gobierno a través de la consejera tapia

no hay la más mínima duda sobre el compromiso de siemens gamesa con euskadi entonces yo le pregunto a usted porque ha estado reunido con la empresa siemens acompañando a la señora tapia

no es necesario que haga públicamente nada cuando he estado reunido como usted bien dice

ag y efectivamente sí el día cuatro de abril mantuve una reunión con el presidente de siemens ag

en la que participaron la presidenta de siemens gamesa y la consejera de desarrollo económico e infraestructuras del propio gobierno vasco

su compromiso de permanencia en euskadi y de cumplir íntegramente el acuerdo de fusión y también el compromiso de reforzar los centros de decisión en zamudio a través de siemens gamesa y también en zumaia a través de siemens engine business

reconoció durante el primer año como cualquier proceso de fusión empresarial debe superar durante los primeros años dificultades a las que se han añadido también los problemas de mercado que afronta la nueva entidad

lo que había sido la evolución de siemens gamesa en el mercado internacional con los competidores globales incluso también con la caída del mercado en india o con la caída del mercado a nivel internacional y el incremento

mantenemos información actualizada de la evolución de la empresa y de los ámbitos de colaboración

eólica y el plan de vinculación con empresas proveedoras y centros tecnológicos vascos por ejemplo es el camino para mantener el anclaje efectivo de siemens gamesa

puede que sea necesaria en ocasiones pero nunca es una buena noticia no es una buena noticia la señora tapia ha destacado en más de una vez el arraigo que

no tiene arraigo tiene interés lo ha demostrado el capital internacional

el capital no tiene arraigo solo tiene interés y a los hechos me remito el quince de febrero pasado siemens gamesa ha presentado un plan de negocio para los años dos mil dieciocho a dos mil veinte en los que prevé mejorar un diez por ciento el beneficio a costa de recortar los costes en dos mil millónes de euros

recortar los precios a los proveedores en un veinte por ciento y yo le digo cuáles son las consecuencias para euskadi de esto cuáles son las consecuencias para las ochocientos empresas que son proveedoras de siemens gamesa tienen que reducir sus costes un veinte por ciento en dos años

cómo lo van a hacer se lo digo yo a costa de las plantillas como siempre a costa de las plantillas o de los cierres mire el

apenas quince días después de que se oficializara la fusión dijo muchos tenemos claro el desarrollo de este acuerdo que este acuerdo tendrá en el futuro

las centrales de compras se desplazarán hacia alemania y el capital humano que es el mayor activo de gamesa

todavía piensa que no es necesario hacer una declaración pública con esto

qué más declaraciones públicas que las que ha hecho la propia consejera de desarrollo económico e infraestructuras mire señor becerra hemos hablado muchas veces de lo que es el mercado mundial el mercado global la globalización

de las preocupaciones sobre lo que es la reflexión o la preocupación sobre el arraigo de las empresas con capital extranjero y qué me dice del compromiso de las empresas con capital vasco en el exterior

no no no hablamos del mercado global o no hablamos del mercado global

en lo que es la decisión de mantener el arraigo de las empresas aquí que es por lo que usted me ha preguntado mire conozco las informaciones relativas a eventuales problemas como accionista de referencia y yo no voy a entrar en cuestiones que corresponden al ámbito interno de relaciones accionariales de gestión

que usted ha mencionado en su primera intervención como accionista significativo empresa

empresa que ha dado pruebas también de su interés como accionista de referencia por garantizar el anclaje

y el gobierno está en contacto y trabajando conjuntamente con la empresa desde el departamento desde el ente vasco de la energía desde el clúster de energía

que potencien la actividad de la empresa en euskadi y su capacidad tractora de nuestra economía

en proyectos de industria cuatro punto cero en generación eólica y en puesta en marcha de nuevas startups o la participación de la empresa en el programa de emprendimiento bind cuatro punto cero

y los centros de decisión aquí en euskadi eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

bai mila esker egun on guztioi teniendo en cuenta el informe del consejo económico y social vasco sobre el

señor lehendakari nos gustaría saber qué modificaciones

indicando cuáles han sido las cuestiones que hemos contemplado en el borrador del séptimo plan de igualdad antes incluso del informe del consejo económico y social eskerrik asko

eskerrik asko lehendakari jauna bueno vuelve a poner piloto automático

una y otra vez en cada una de sus intervenciones y que no acaban de materializar lamentablemente

tras treinta años de políticas de igualdad la sociedad vasca es otra

un tiempo nuevo y ustedes insisten en la misma receta el informe del consejo económico

para que hagan un poquito de autocrítica y eso que como se cita en el informe la tramitación por urgencia ha impedido tener el tiempo suficiente para abordar con la profundidad que merece

de haber hecho un mínimo gesto de escucha y revisión ustedes optan por salir rápidamente a tirar balones fuera a irse por las ramas a desviar la atención del problema de fondo que si un plan orientativo que si las competencias que si las instituciones eligen estrategias de intervención que el presupuesto va aparte para qué piden el informe

y alarmante según la directora de emakunde en euskadi

invierten un total de treinta coma ocho millónes de euros anuales en igualdad

es la esquinita de la esquinita de la foto que diría mi compañera la señora arana la inversión per cápita en igualdad es de catorce euros

catorce euros por cada habitante de euskadi son los presupuestos generales del estado buenos también para las mujeres vascas y para la igualdad en euskadi señor lehendakari sabe qué nos dijeron también en onu mujeres y que olvidó mencionar en el pleno anterior que le exijamos

y que no vale la excusa de la transversalidad con esta batería de respuestas con este debate metodológico cuasi metafísico que nos ofrece mareando la perdiz sobre lo que debe o no debe contener un plan nos vuelve a confirmar su poca ambición voluntad y compromiso con las políticas de igualdad

y es que este informe es un elemento más para reafirmarnos en lo que ya hemos manifestado en varias ocasiones en este parlamento y mientras se siga dando la misma respuesta

porque el gobierno vasco va a rebufo descolocado y a nivel institucional no ejerce el liderazgo que le corresponde les falta altura de miras para responder al nuevo tiempo

tenemos un plan lleno de objetivos y carente de medidas concretas pero usted llama medidas a objetivos rectificar

pero es que además es necesario que lo haga para tener unas políticas de igualdad que verdaderamente respondan a los desafíos que plantea este nuevo tiempo y las mujeres vascas

permítame con toda modestia hacerles el planteamiento a ustedes de que es una tónica en ustedes

mire yo no voy a dejar tentarme tan siquiera de poner en cuestión ni la solvencia de determinados informes ni la metodología de trabajo ni la dinámica de trabajo

y se aprobará en unos meses y que respetamos y que valoramos las aportaciones del consejo económico y social realizadas a solicitud de emakunde

propuestas por este organismo eso sí en el momento en que corresponda que es el despliegue del plan director a los programas concretos de cada institución

con un programa de actuación que compromete unas iniciativas y presupuestos concretos así lo exige la ley

el plan de igualdad asegura que todas las administraciones públicas trabajen en una misma dirección y para la consecución de unos mismos objetivos y a continuación cada institución es responsable de diseñar su programa o programas de actuación señora macazaga son estos programas ahora sí en ese momento

las personas responsables y los presupuestos a ejecutar el objetivo del plan de igualdad no es definir actuaciones concretas para el gobierno las diputaciones o los ayuntamientos el plan nunca ha incorporado un contenido económico el plan señala los objetivos

y las prioridades para los próximos años objetivos que deberán ser desarrollados en los ámbitos institucionales con cargo a sus presupuestos será en ese momento

reitero y lo que usted olvida pero el plan de igualdad demuestra es que en euskadi la planificación en materia de igualdad está ampliamente desplegada que todos los departamentos del gobierno las tres diputaciones forales y ciento dieciocho ayuntamientos que aglutinan el ochenta y tres por ciento de la población disponen de un plan de igualdad vigente

que euskadi invierte por encima del entorno que el gasto ejecutado en materia de igualdad por las administraciones vascas en dos mil dieciséis fue sí de treinta coma ocho millónes de euros que euskadi cuenta con una estructura organizativa estable responsable de aplicar los programas en favor de la igualdad y que todos los departamentos del gobierno de las diputaciones y ciento nueve en este caso ciento nueve ayuntamientos cuentan con una unidad de igualdad

sin parangón en nuestro entorno y de hecho ocupamos el quinto puesto en el ranking de países europeos en igualdad y eso lo sabe usted muy bien también señora macazaga y esta sigue siendo una prioridad institucional y social ustedes señora macazaga critican nuestras políticas pero paradójicamente esta misma semana

y el mismo gobierno que para sus compañeras es una referencia a conocer en profundidad es para usted un objeto de crítica permanente pregunte a sus compañeras eskerrik asko

galdetzen dugu igual no estoy tan de acuerdo con una parte del diagnóstico porque creo que son las dos caras de la misma moneda es decir

porque como usted muy bien sabrá para madrid foronda es un aeropuerto de categoría tres

para ese aeropuerto como usted muy bien sabe además

manejar un número de criterios superior y hacer valoraciones que no solo afecten a pasajeros sino que afecten a carga el hecho de que también foronda sea categoría tres para aena hace que foronda no sea un aeropuerto

de que no les interese y que tenga que estar agrupada con otros aeropuertos lastra también el propio desarrollo de foronda usted sabe que en estos momentos

en foronda y esa es una decisión que tiene que ver con la categorización que se da desde madrid es decir hay

que colaboren creo que se queda corto porque lastra normalmente la situación

y lo que supondría desarrollo económico para el territorio es decir es fundamental para hacer determinados tipos de planteamientos en estos momentos que no haya significa que no se pueden desviar aviones de pasajeros por ejemplo porque no se puede dar ese servicio

del aeropuerto y el hecho de que no se disponga de un hache veinticuatro hay al final

lo que ha supuesto a su vez pérdida de cargueros con lo cual tiene

sobre todo un diagnóstico de este tipo nos lleva a una única solución que es la transferencia

con lo cual tenemos un coste de oportunidad muy grande el hecho de que no se esté produciendo la transferencia de aeropuertos significa

no al aeropuerto sino para todo el territorio tenemos además que

tenemos una serie de cuestionamientos en el desarrollo económico que tienen una única solución que es

que tengamos realmente la competencia tal y como está recogido por eso le vuelvo a preguntar quizás porque no me ha quedado claro sabemos qué es lo que no está haciendo el gobierno de madrid es prioritario desde luego desde nuestro punto de vista otras muchísimas cosas de transferencias pero qué es lo que ustedes van a hacer para que podamos conseguir la transferencia de aeropuertos y podamos hacer el desarrollo

sí gracias señora presidenta señores consejeros señor arriola buenos días

popular sobre el problema de abastecimiento que afecta al valle de zuia y al ayuntamiento de urkabustaiz existe documentación sobre este asunto en esta casa en las juntas generales de álava y en los propios ayuntamientos afectados

hace más de treinta años y que a día de hoy siguen sin una solución el problema no debe ser fácil de solucionar pero también una vez repasada la diversa literatura que existe se puede apreciar que el interés

de las diferentes administraciones competentes ha sido cuando menos

y muy condicionado por intereses cercanos o previos a periodos electorales

principalmente en los meses de verano parece que en dos mil seis fue

a la mayoría de los afectados era la creación de una balsa en el término de markina y que se entendía como la solución más adecuada o la más

de ser ejecutada ya que otras soluciones barajadas eran de un coste elevadísimo esta es ratificada en los plenos municipales de los distintos ayuntamientos y donde se aprobó por unanimidad ratificar el anteproyecto del alto bayas para el abastecimiento

vasco por ejemplo el acta del ayuntamiento de zuia dice así la corporación municipal acuerda por unanimidad ratificar dicho proyecto solicitar a la dirección de aguas urak todavía no se había creado

del citado proyecto ante la situación de alerta que sufre en municipio de zuia en el servicio de abastecimiento de agua en la época meses de junio julio agosto y septiembre y manifiesta a la dirección de aguas la disposición total del ayuntamiento para realizar cuantas acciones sean precisas

hacer efectivo el mencionado proyecto año dos mil seis

también los presupuestos generales del estado contemplan una partida presupuestaria acordada por el grupo socialista el gobierno socialista del señor zapatero y del grupo nacionalistas vascos en la que incorpora una partida de un millón quinientos mil euros

partida que se repetía en los ejercicio dos mil siete bi mila zortzi bi mila bederatzi bi mila hamar bi mila

partida que nunca se ejecutó un engaño a los ciudadanos por la que nunca mostraron interés

proponente de esta partida también al mismo tiempo el ayuntamiento de zuia en el mismo año dos mil seis edita su boletín municipal para los vecinos

y la solución proyectada consiste en la construcción de una infraestructura de abastecimiento necesario para garantizar al menos una dotación de diecinueve coma doce litros segundo para el municipio de zuia y de cinco coma ocho litros segundo para urkabustaiz

reguladora de cuatro hectómetros cúbicos en el actual depósito de santa marina en la zona norte de sarria parecía que todo estaba muy concreto y así lo debía

del grupo político que gobernaba en aquel momento es también en el año dos mil seis cuando el ayuntamiento de zuia termina la modificación de las normas subsidiarios del planeamiento y sobre el cual el departamento de urbanismo

suspender la aprobación definitiva de la revisión de las normas subsidiarias

no se subsane la deficiencia consistente en garantizar el suministro de agua necesaria para satisfacción de las necesidades del modelo territorial propuesto en las

en quinientos viviendas si no había agua antes y había escasez el aumento de estas quinientos viviendas ponía en cuestión el abastecimiento de la población de esos ayuntamientos el veinticuatro de abril de dos mil siete desde la viceconsejería de medio ambiente y ordenación del territorio

donde se habla del proyecto del alto bayas del calendario de ejecución del presupuesto del proyecto

que estará en condiciones de licitar las obras de construcción en febrero

para lo cual ya estaban hechas las reservas presupuestarias necesarias este documento tiene por objeto justificar los compromisos necesarios que hagan posible el suministro de agua que se necesita para la presente para la propuestas que se recoge en el documento de revisión de las normas es decir la dirección de aguas presenta este proyecto para garantizar

ponía porque no había no estaba ese proyecto y la garantía de suministro para la propuesta de esas quinientos viviendas ante estos datos diputación foral de álava considera que si la obra tal y como dice la

y estará en condiciones de suministrar agua a las nuevas quinientos viviendas que se proponen en las normas subsidiarias

qué ha pasado pues nunca se han ejecutado y si eran necesarias hace treinta años y si hemos

pues sin duda hoy son mucho más necesarias la población en estos ayuntamientos en los últimos veinte años ha crecido un treinta por ciento

un nuevo proyecto nos decían que nunca se presentó y no llegó a comprometerse con una solución de abastecimiento para zuia señor consejero en dos mil catorce

y salió aprobada en la que instábamos al gobierno vasco a que licite con carácter urgente las obras del proyecto constructivo del abastecimiento de zuia urkabustaiz

constructivo del abastecimiento de zuia urkabustaiz esto se aprobó en esta cámara es verdad que el grupo nacionalistas vascos

esa partida presentamos una enmienda a los presupuestos que no fue aceptada resumiendo señor consejero dos mil dieciocho estamos

en el año ochenta y cinco que la población ha crecido que seguimos actuando y viviendo

húmeda pero que no se recoge el agua con lo cual no hay posibilidad de mantener agua para esos meses de verano y yo le pregunto señor consejero tiene usted idea de qué va a hacer va a tomar alguna decisión de empezar esta

este compromiso del gobierno del dos mil siete usted ha asumido

la dirección de ura dentro de su departamento y esa dirección tiene

las ha asumido por lo tanto entiendo que estará entre sus proyectos acometer esta obra de abastecimiento para el ayuntamiento de

y qué plazos maneja cómo va a afrontar hacer esta infraestructura tan necesaria para esta

gracias señora presidenta señora lópez de ocariz me pregunta usted en su interpelación si tengo el propósito

como si este consejero tuviera una especial inquina con este proyecto

del departamento de medio ambiente desde tiempos inmemoriales lo que evidentemente no es el caso

ha recordado efectivamente en su intervención diversos hitos

de abastecimiento de agua a los municipios alaveses de zuia urkabustaiz permítame que en esta primera intervención complete la historia

de las circunstancias que han rodeado esta cuestión hasta el día de hoy ya en el año mil novecientos ochenta y cinco

por encargo de la diputación foral de álava se encarga el estudio de recursos hídricos

en el que como alternativas de aprovechamiento se planteaba la posibilidad de establecer cuatro cerradas

dos en su cabecera y dos en su curso medio terminado este trabajo no se dieron más pasos hasta que nuevamente se plantea actuar a raíz de la sequía del periodo mil novecientos ochenta y nueve

así la diputación encarga formalmente un estudio de posibilidad de regulación del rio bayas

con unas propuestas de infraestructuras un tanto excesivas yo diría que bastante excesivas

de mil novecientos noventa y ocho aunque no se ha llevado a cabo ninguna actuación por motivos previsibles de elevado impacto medioambiental y social

agravados por las desmesuradas dimensiones del dique que se proponía entre tanto el crecimiento residencial de muy baja densidad que como usted comentaba ha venido produciéndose en el entorno ha traído y trajo como consecuencia

el uso indeseado de las aguas de rio bayas por el riego de numerosos jardines prados césped etcétera

razonable de la demanda en los meses de estiaje la extracción masiva de agua afecta de forma crítica al estado ecológico de un rio con valores singulares

esto llevó a cabo al gobierno vasco a hacer un seguimiento de la situación

proteger y mejorar el estado ecológico de la masa de agua afectada en un entorno natural de gran valor y al mismo tiempo

de abastecimiento urbano para ello en marzo de dos mil cuatro

un año después en diciembre de dos mil cinco como usted comentaba en la ley de acompañamiento de los presupuestos generales del estado para el año dos mil seis

urkabustaiz obra de interés general del estado y se la dota de una partida de setecientos cincuenta mil euros

esta infraestructura en mayo de dos mil seis

la aprobación de la alternativa seleccionada en el estudio de alternativas y anteproyecto de abastecimiento del alto bayas

a la contratación del proyecto constructivo y de los documentos complementarios como el estudio de impacto ambiental

el mismo director de aguas envía a la oficina territorial de álava un informe de las previsiones de abastecimiento en el término municipal de zuia en el que da cuenta de los plazos estimados

la ejecución de las obras y la puesta en marcha de las nuevas infraestructuras dado que a pesar de que

el gobierno vasco sigue con su tramitación y en diciembre de este año envía a la dirección del parque natural de gorbeia

ya que existen posibles actuaciones en el interior del parque

de las que se definen y se desarrollan las cuatro más favorables la

entre todos los puntos analizados donde el técnico ambiental como económico es una toma en la cuenca alta del río y una presa reguladora de moderadas dimensiones

y además de la presa en el proyecto se incluye las captaciones de las actuaciones la estación de tratamiento

en alta a la vista de la información aportada

concluye mostrando la conformidad al emplazamiento de la balsa elegido porque parece que es el mejor entre todos los estudiados y el que menos impacto ambiental genera entiende que las actuaciones serían autorizables

pero dice lógicamente que el proyecto constructivo deberá ser sometido a trámite de evaluación de impacto ambiental en los términos que establece la legislación vigente asimismo que este proyecto constructivo definitivo debería ser presentado al órgano responsable de la del parque a fin de que el mismo

como consecuencia de ello el veintinueve de diciembre del dos mil seis el gobierno vasco saca a concurso la redacción del proyecto constructivo de abastecimiento del alto bayas contrato que se suscribió el veintitrés del dos mil siete paralelamente el veinticuatro de enero del dos mil siete el directo de aguas remite un escrito a los ayuntamientos de zuia y urkabustaiz

y el veinticuatro de abril de ese mismo año la entonces viceconsejera de medio ambiente y ordenación del territorio

de urbanismo y medio ambiente de álava de los trámites para contratar la redacción del proyecto y la estimación de que la licitación de las obras de construcción podría producirse en febrero del dos mil ocho sin embargo el contrato de elaboración del proyecto constructivo fue objeto de una suspensión temporal y de una ampliación de plazo en abril del dos mil ocho

de regulación de este tipo en un medio natural tan sensible en los primeros meses de andadura de ura

el documento inicial del estudio de alternativas y el anteproyecto de abastecimiento de alto bayas para someterlo a evaluación ambiental finalizado el plazo de consultas y una vez analizadas las

entonces dirección de planificación de evaluación y control ambiental

amplitud y nivel de detalle del estudio solicitando datos adicionales en abril del dos mil diez se reanudan los trabajos de elaboración del proyecto constructivo de abastecimiento del alto bayas que finalizan en octubre de ese año

la información pública de solicitud del gobierno vasco sobre la concesión de aprovechamiento de agua precisa

se licita la contratación del estudio de alternativas de ampliación del proyecto de abastecimiento del alto bayas

del órgano ambiental establecidos en el procedimiento de evaluación individualizada

inicia sus trabajos a partir de esta fecha el proyecto entra en la fase de congelación en una fase de congelación

como consecuencia de la crisis económica se paralizan todas las inversiones no urgentes

en este caso estamos hablando de una obra que para mejorar la cobertura de las necesidades de abastecimiento de los

muy elevado el último coste estimado es de dieciocho millónes de euros en este relato lo he descrito las causas del retraso del comienzo de este proyecto pues se encuentra técnicamente finalizado aunque lógicamente

tengo que decirle que los trámites administrativos y ambientales pendientes

caducara la declaración de impacto ambiental a los dos años obligando a repetir el proceso respondiendo a su pregunta la respuesta es que este gobierno no ha tenido ni tiene el propósito de demorar

en cuanto sea factible teniendo en cuenta entre otros factores la disposición de recursos económicos la entidad del problema a resolver y el balance coste beneficio en términos sociales económicos

pero sí que usted ha asumido este departamento como le decía antes con todas las cargas que tiene de ejecución pendientes por lo tanto la elección que usted ha hecho creo que habrá sido libre y usted

y con estas cuitas que vienen añadidas ya lo siento yo le decía lo de demorar porque mire este debate como le decía antes se ha suscitado en esta cámara pero también en las juntas generales de álava

decía lo siguiente decir que el proyecto está en estos momentos redactado que saldrá

saldrá la información pública la financiación también se puede decir que es

y terminará en el año dos mil veinte con diez millónes de euros hay un proyecto y está trazado es un acuerdo del gobierno vasco

un procurador en juntas del grupo socialista por eso le digo si ustedes que deberían de tener un conocimiento muy exacto de la evolución y cuándo iba a estar acabado

no sé lo hable usted con sus procuradores este procurador fue en su momento concejal del ayuntamiento de zuia y yo creo que se estará atendiendo a algún no se habrá inventado esta historia por eso le decía lo de demorar que parecía que en el dos mil quince estaba en condiciones de ser ejecutado

agua abundante pero que carece de infraestructura para almacenamiento para esa

y urkabustaiz el gobierno vasco se comprometió por escrito en el año dos mil siete a solucionar este problema y usted me dice no me haga responsable es responsable del gobierno

es un incumplimiento que se va arrastrando durante treinta años y usted también lo ha relatado por lo tanto es un incumplimiento más de los muchos que acumula el gobierno vasco en tema de infraestructuras hidráulicas en la legislatura anterior desbloqueamos

el saneamiento de urdaibai que llevaba otros treinta años

también con retraso por lo tanto es un hábito de este gobierno el retrasar estas obras por qué porque no hay una apuesta decidida presupuestaria para

más amplia y con mayor dificultad para poder afrontar

yo le quiero decir que en la comisión de seguimiento del acuerdo marco de infraestructuras hidráulicas del tres de febrero

esto en el dos mil once en el gobierno del señor lópez que había un proyecto hecho que había un estudio

y dijo que iba a acabar en el dos mil doce es que de verdad es que ustedes que también gobernaron también incumplieron

parece ser que no estaban en condiciones de afrontar por lo tanto cuando dice usted me reprocha que si voy a seguir demorando claro que están demorando lo demoraron en su día por qué porque hacen anuncios que no están respaldados

para contentar al ciudadano porque no están respaldados con la suficiente documentación

unos y otros han venido vendiendo vamos a empezar las obras en el dos mil ocho luego en el dos mil doce luego nos dicen que en el dos mil quince y ahora le pregunto señor consejero

toda la documentación cree usted que va a estar dispuesta tanto la documentación técnica como la presupuestaria

las obras para asegurar el abastecimiento a la población igual que el sarmiento no es una competencia de ura

como ayuda a los entes competentes que son los municipios

solo por precisarlo sin más pero lo que sí le tengo que decir es que ura tiene un compromiso

se cumplirá lo vamos a cumplir en mi primera intervención le he dicho que teníamos voluntad de cumplirlo y ahora se lo ratifico

el gobierno vasco a través de ura ha concluido recientemente la construcción de la depuradora de aguas residuales

muy recientemente con un presupuesto que superó ampliamente los siete millónes de euros

hay voluntad y lógicamente vamos a avanzar en el cumplimiento de este objetivo pero es que

del año pasado el departamento ura y la depuración foral de álava

un acuerdo en el que se actualizaron y se ampliaron compromisos contemplados en el anterior al de dos mil cuatro

convenios y no cumplen efectivamente yo soy heredero de todo eso pero

en base a la capacidad de gestión y económica el desarrollo de los objetivos llegando a acuerdos

para que no generemos expectativas que no se cumplen y para que podamos en base a las capacidades

en base a las prioridades lo que es la inversión en materia hidráulica

incluye el abastecimiento del alto bayas

y ese horizonte es el horizonte que va entre veintiuno y el veintisiete aquí

señora me pregunta usted cosas que están aprobadas ya y que están recogidas hace unos pocos meses en un acuerdo marco por la diputación foral de álava qué quiere usted que le diga qué quiere que le responda le respondo lo que hay

le digo la realidad esto es lo que está firmado y lo que está escrito y en el marco de este compromiso

se abordarán cuanto antes a propósito

en la comisión ustedes han tenido la posibilidad de negociar con el gobierno la aprobación de los presupuestos del diecisiete y del dieciocho

han priorizado y han introducido enmiendas que han supuesto incrementos de gasto no será para ustedes tan prioritaria la ejecución de esta infraestructura

está claro que una cosa es predicar y otra es dar trigo y aquí es cuando se ve realmente dónde está en interés

la vocación de que las cosas se acometan evidentemente esta es una situación que viene de la historia larga historia desde el año ochenta y cinco

y la realidad que tenemos es esta y hay un horizonte en el que efectivamente

en base a la revisión que se ha realizado de esos compromisos con la diputación foral de álava y aquí hay un acuerdo marco que firmamos la diputación

en primer lugar en el horizonte dos mil diecisiete dos mil veintiuno

y efectivamente esa actuación está prevista en el veintiuno veintisiete

bueno buenos días a todos los presentes vamos a ver

quiero empezar esta interpelación a la señora consejera

conoce pero vamos a empezar con los positivos para evitarnos ese reproche

y me voy a referir a los datos que se deducen de los resultados de las pruebas de acceso a la universidad y la fuente es un estudio de la consejería gallega que nos viene muy bien porque hace una comparación con todas las autonomías españolas a ver qué está bien los resultado en matemáticas pues mire en matemáticas vamos bien la media es

no está mal en física la media es once coma uno y nosotros tenemos un catorce coma treinta y cinco

química la media es un diez coma trece y nosotros tenemos un quince coma sesenta y siete también está bien biología la media es un trece coma veintidós aquí empezamos ya a fallar tenemos un doce coma noventa y uno

la media es un trece coma ochenta y ocho y volvemos a estar por debajo un trece coma ochenta y tres pero lo que ya lo que ya es verdaderamente alarmante y que nadie me diga que no he empezado a reconocer las cosas que no están mal

es que en literatura y lengua española la media es un ocho coma noventa y uno la autonomía que saca una mejor nota es un treinta y dos coma nueve y saben cuánto saca la comunidad del país vasco un cuatro coma noventa y nueve

y a ver esto es alarmante porque estamos hablando de lengua y literatura

en cambio hay un dato que es

que es los resultados que conseguimos en la materia homónima en euskera estamos consiguiendo buenos resultados pero con una preocupación y es que poco a poco vamos descendiendo

y este es el problema al que nos enfrentamos hoy y ya vamos a ir todavía datos globales hemos analizado por asignaturas

la media de nota en el país vasco de la selectividad fue seis coma tres por debajo de la media estatal que era seis coma cuarenta y cinco

fue del setenta y seis coma veinticinco estoy hablando de lengua y literatura castellana es decir algo más de tres cuartas partes pero es que la media estatal es de ochenta y dos coma veinte volvemos a estar bastante por debajo

dos lenguas cooficiales porque por ejemplo cataluña también con lengua cooficial pues la media la nota que sacaron fue ochenta y tres coma ocho por encima de la media estatal entonces este es el problema

qué va a hacer su departamento para corregir estos resultados porque el problema que tenemos con estos resultados es la tendencia

mire yo me conformaría con que los resultados del año dos mil dieciocho

porque al fin y al cabo una foto fija no es

pero no nos habla de un desarrollo yo es que me conformaría con que fueran superiores pero si vamos hacia abajo eso es lo que es verdaderamente preocupante sé que me va a decir usted que

en general de la prueba de selectividad lo de lengua y literatura que otras comunidades pues puede ser pero si es base a medianías si es en base a conseguir medianías

porque esa es una nota que va a valer para

estudios universitarios entonces usted siempre dice que buscar la excelencia es uno de los principios que rigen su consejería entonces si estamos hablando de que aprobamos sí pero aprobamos con notas inferiores a la media

lengua y literatura española pues yo no me conformo y creo que no se debiera conformar

sabiendo además el esfuerzo económico que estamos haciendo

es la mediocridad vamos a llamarlo mediocridad creo que es más gráfico si la mediocridad es generalizada que tenemos

un cuatro por ciento y tenemos el porcentaje más bajo de alumnos excelentes otro cuatro por ciento

un diez por ciento de alumnos excelentes nosotros solo tenemos un cuatro por ciento por ello señora

la interpelación que le formulo cuáles son los propósitos del departamento de educación en relación con las políticas educativas

literatura en el sistema educativo vasco porque le recuerdo
quince puntos por debajo de la media muchas gracias eskerrik asko bengoechea andrea

eskainitako irakaskuntza zehatz batzuen inguruan egiten da en este sentido el pasado dos mil diecisiete en euskadi se matricularon en las pruebas de acceso a la universidad doce mil novecientos cuarenta y ocho estudiantes dentro de las diversas modalidades referenciadas de los cuales once mil ciento veinte se matricularon en la convocatoria ordinaria que es la que usted ha tomado de referencia para esta interpelación

a las pruebas un noventa y siete coma sesenta y nueve por ciento del total

es decir un noventa y cinco coma ochenta y tres por ciento la mejor cifra de todas las comunidades autónomas y casi nueve puntos por encima de la media estatal

estando incluso por encima del dato facilitado anteriormente y llegando al noventa y siete coma ochenta y cinco por ciento de nuevo el mejor dato a nivel estatal esto significa que de cada cien alumnos procedente de bachiller presentados a la convocatoria ordinaria aproximadamente el noventa y ocho aprueba la prueba

en el estado de media la suspenden cerca de ocho estudiantes es importante contextualizar estos datos para trasladar una realidad objetiva y objetivable que es que nuestro alumnado en su última etapa educativa de manera global e integral obtiene mejores resultados que en otras comunidades autónomas de cara a afrontar sus retos futuros en este caso la etapa universitaria

obtenidos en una de las asignaturas de la fase general como bien he explicado al inicio de mi intervención

especifica pero usted se centra únicamente en la asignatura de lengua castellana y literatura

no son comparables muchas de las asignaturas que usted ha comparado en las distintas informaciones que ha ido citando en este punto debo decirle que la condición de nuestra comunidad

es decir como una comunidad bilingüe con un sistema educativo que desde nuestro bilingüismo aspira a conseguir en el alumnado un suficiente desarrollo de la competencia lingüística plurilingüe por ello desde este gobierno y así se recoge en nuestro programa de gobierno

con la progresiva evolución hacía un sistema educativo plurilingüe básicamente trilingüe

por esta razón todas las iniciativas para mejorar la competencia en comunicación lingüística del alumnado se realizan desde un enfoque de tratamiento integrado e integral de las lenguas para aprovechar y rentabilizar en el alumnado la transferencia de lo aprendido en una lengua para el aprendizaje en la otra

el currículo de educación básica y se implanta en la comunidad autónoma del país vasco

con el objetivo de desarrollar una competencia comunicativa plurilingüe

lo que le es propio y compartir entre todas lo que tienen en común siempre al servicio de que el alumno o alumna pueda utilizar de manera adecuada y eficaz la lengua que requiere cada situación

a partir de este principio reflejado en los sucesivos decretos curriculares de la comunidad

se realizan bajo el paraguas de este enfoque por lo que en su mayoría son propuestas que recubren la enseñanza y aprendizaje de las dos lenguas oficiales de manera indistintas

que por tener unos objetivos y un nivel diferente a las dos lenguas oficiales en este sentido y utilizando su propia argumentación

esto es la lengua castellana y literatura la lengua cooficial en las comunidades autónomas que procede y la lengua extranjera en este caso hablamos del inglés objetivamente y basándonos en su mismo informe de referencia somos la comunidad autónoma que obtiene la mejor nota de aquellas que tienen lengua cooficial con un punto por encima de la media estatal calificación de siete coma sesenta y seis frente al seis coma cuarenta y seis de media objetivamente

nota de todas las comunidades autónomas en la asignatura de lengua extranjera en inglés casi un punto por encima de la media estatal calificación de siete coma cuarenta y cuatro

y con el menor porcentaje de suspensos un nueve coma cincuenta y uno por ciento frente al veintitrés por ciento de la media estatal un tema señora bengoechea

y que nos consta que les preocupa por último es importante recordar

de lengua castellana y literatura son mínimas en la mayoría de los casos y por tanto

así de las diecisiete comunidades doce de ellas entre las que se encuentra la nuestra están en una horquilla que va desde los seis puntos a los seis coma cinco puntos

sin menoscabo de las medidas específicas de mejora de aprendizaje de la lengua castellana que le comentaré en mi segunda intervención

pues señora consejera créame que estoy deseando

por una razón porque es que en su primera intervención lo que ha venido a decir es que no hay ningún problema

para alarmarnos por nada a ver yo he sido la primera que al empezar esta intervención he querido poner de manifiesto aquellas cosas

estamos yendo bien porque me parece de justicia pero de lo que estamos hablando aquí es de lengua y literatura castellana no estamos hablando de euskera que sé que hemos sacado buena nota como usted ha dicho y luego

que la metodología tampoco se busca la excelencia

cualquiera que sepa algo de euskera sabe que una lengua no solamente ordena la comunicación

la producción de ideas por eso el euskera es tan diferente al castellano

y hablando en castellano no solo se habla se piensa diferente

particularmente más complicado se trasvase

conocer tanto bien el euskera y cómo pensamos en euskera eta nola jarri behar dugun galdegaia eta nola

pasa lo mismo entonces teniendo la riqueza suficiente para tener

lo que no podemos decir es que sencillamente aprendemos una lengua para trasvasar conocimientos a otra no tenemos que aprender las lenguas bien porque nos amplían la capacidad

y usted parece que no encuentra ningún problema a que estemos quince puntos por debajo de la media cuando ya le digo que no es tanto un problema de cooficialidad porque los niños catalanes están bastante por encima de la media en lengua y literatura castellana que es de lo que estamos hablando

y vamos a hablar de literatura mire muchos aprendimos a amar el euskera leyendo la lírica vasca del siglo dieciocho

cómo nos contaban la última ballena de orio hain politak ziren kontu

y la literatura sirve también para amar la lengua entonces no solamente sirve para amar la lengua sino para tener consciencia de un devenir de ese grupo que lo ha hablado

yo no entendería igual en euskera lo que ha sido el devenir si no conociera la canción de la cárcel de ese pobre mila zortziehun eta hamabostgarrena ni preso hartu nindutena ese pobre hombre que lo meten a la cárcel

tantas historias que nos ayudan a meternos en lo que es nuestra propia comunidad

siendo nosotros también una comunidad castellanoparlante yo le pido por favor porque creo que en usted ya es una cosa de suplicar porque claro es que usted

entonces por favor le pido que nos abra esos mundos

y las distintas literaturas porque todo eso es bienestar y satisfacción

por favor hagamos un esfuerzo quince puntos por debajo de la media nosotros no nos consolamos eskerrik asko

señora bengoechea yo creo que no es cuestión de consolación o no consolación a ver

mejorar la competencia en lengua y literatura yo lo único que le he dicho es que en esta comunidad autónoma teniendo dos lenguas cooficiales y una apuesta también muy seria por una tercera lengua extranjera que básicamente es el inglés tenemos

un procedimiento en el que hacemos un tratamiento integrado e integrado en las lenguas y en eso

sino simplemente que utilizando el aprendizaje en las tres lenguas avanzamos en el resto también de las competencias es decir utilizando lo de una y de otra lo que hacemos es aprender las tres lenguas pero a su vez aprendiendo el resto mejorando el resto de las competencias es decir no son compartimentos estancos o sea no sé si usted

usted se ha centrado en lengua porque vale ve que hay un dato que realmente y de acuerdo sabemos que es uno de los datos que tenemos mejorar pero lo que tampoco puede es soltar aquí un montón de datos que dependiendo además de dónde se cojan pueden darse una interpretación y otra

dato de la asignatura de historia de españa pues estamos por encima de la media española sí señora

que usted misma ha sacado estamos por encima de la media oficial española

y estamos por encima de galicia por eso me extraña usted el dato que ha sacado le estoy diciendo que es exactamente de la estadística oficial que usted me ha sacado

tenemos un montón de asignaturas y tenemos un porcentaje de aprobados y la gente llega a la universidad y sigue estudiando es decir somos conscientes de que hay que tomar medidas para mejorar y no nos queremos conformar con la mediocridad y por eso seguimos trabajando

según qué estadística me convenga utilizo una u otra es decir

un poco de consecuencia a mí también ya me gustaría que tuviéramos

con intensidad en la primera intervención es decir nosotros partimos de que tenemos dos decretos

en el que establecemos curriculum de educación básica y educación infantil

se introduce el tratamiento integral integrado de las lenguas es decir

y entonces cómo avanzamos en la adquisición de todas las competencias además también de estas

que durante los últimos cuatro años ha sido la punta de lanza de una de las líneas estratégicas del departamento

como documento que permite reunir y dar coherencia a todas las decisiones del centro en relación a la organización y al aprendizaje de las lenguas

supone de facto tomar medidas para la mejora del aprendizaje de lengua castellana del mismo modo la oferta formativa que se desarrolla en todos los cursos bajo el programa prest gara

que van dirigidos al profesorado en lengua en general independientemente

castellano y siempre desde el enfoque del tratamiento integral e integrado de las lenguas adicionalmente

que desarrolla un plan de formación en centros que contempla el desarrollo de cinco módulos de formación dos de ellos comprensión lectora ligado al desarrollo de la competencia básica transversal

y el tratamiento integrado de las lenguas ligado al desarrollo de la competencia básica disciplinar competencia lingüística y literaria

desde el enfoque del tratamiento integral integrado de las lenguas así mismo

por último también podemos citar en relación con las iniciativas ligadas a la formación del profesorado

y se organizan talleres sobre aspectos concretos de la didáctica de las lenguas en este caso podemos poner aquí como ejemplo la jornada que este año alcanzará la décimoctava

se quitó la vida el pasado mes de marzo estaba recluido en el centro penitenciario

y había sido condenado a veintiséis años de prisión por pertenencia a banda a armada por depósito y tenencia de explosivos y

su intención antes de ser detenido era la de atentar contra policías municipales y forales en la comunidad foral de navarra así como información contrastada y aprobada en juicio contra concejales de upn

y contra algún guardia civil el caso es que afortunadamente fue detenido antes de que pudiera cometer esos asesinatos después de su suicidio

concretamente en la facultad en la escuela de magisterio se celebró este homenaje este homenaje a cargo de estudiantes de decenas de estudiantes probablemente muchos de ellos futuros docentes porque era en la escuela de magisterio en el que con altavoces

como dios manda como le digo esta

la pregunta que le queremos hacer señora consejera es desde entonces hasta ahora cuáles han sido sus actuaciones para que

no vuelva a acoger no vuelva albergar homenajes a

o estén muertos ya sea porque vuelven de la cárcel o porque se han suicidado

señor sémper usted se está refiriendo a un hecho acaecido en el campus de leioa

quiero recordarle que en lo que respecta a las universidades y particularmente a la upv

tiene reconocida una autonomía de actuación que limitan la capacidad de llevar a cabo actuaciones concretas por parte de la administración y más concretamente por parte del gobierno vasco

todo acto de cualquier naturaleza a celebrar en la universidad del país vasco requiere la concesión de un permiso concretamente en el caso de homenajes a presos la upv ehu

en vigor además las personas promotoras de estos actos son conocedoras de este modo de actuar por parte de la universidad y por tanto habitualmente no solicitan dicho permiso evidentemente

no impide que haya personas que decidan organizar actos de forma unilateral y por decirlo de alguna manera clandestina la universidad dispone de personal de seguridad al que corresponde entre otras tratar de evitar este tipo de actuaciones pero también es cierto que no le es posible impedir la organización de todos los actos que pueden hacerse en cualquier momento y en cualquier lugar de la universidad en los que participa muy poca gente como por ejemplo el caso que usted cita

menos de veinte personas tal y como nos han trasladado y cuya convocatoria se promueve a través de redes sociales

que hace todo lo posible que está a su alcance para impedir este tipo de actos tanto en lo que a la normativa se refiere
como a lo que a medios personales se refiere eskerrik asko uriarte andrea

pues señora consejera si le han dicho que asistieron veinte personas pues le han engañado le ha engañado la rectora o le ha engañado quien sea el responsable de haber cometido esa mentira aquí hay yo tampoco estuve pero contar sé

pero aquí más de veinte personas hay yo me atrevería a decir

independientemente de que sean veinte treinta y cinco o ciento cincuenta lo que es una realidad es que teniendo en cuenta efectivamente la autonomía de la universidad pero no deja de ser un espacio público no deja de ser una institución que cuenta con presupuestos

no deja de ser el lugar donde estamos formando a quienes en el futuro van a dirigir este país y que

a nuestros hijos o van a ser responsables de su educación a través de su formación en magisterio es un escándalo nos hubiera parecido un escándalo

en la universidad del país vasco y hubiéramos salido todos y usted seguro que la primera escandalizada nos hubiera parecido un escándalo que hubiera habido una organización que defiende las agresiones a mujeres que hubiera utilizado la upv para justificar

lo que no puede ser es que no sea un escándalo para usted que no le preocupe

el espacio público en este caso la universidad se haya utilizado para esto llámele a la rectora

primero porque es una indignidad y una inmoralidad segundo porque este parlamento se ha pronunciado recientemente contra este tipo de actos y homenajes y tercero porque la universidad no puede ser un lugar en vez de enseñar valores de convivencia de entendimiento se hace homenaje a los hijos y a los padres
de la muerte y el asesinato que es lo que representa y lo que ha eta eskerrik asko

señor sémper yo no he dicho que no me preocupe sino todo lo contrario me preocupa y estoy en continuo contacto con la rectora no le voy a decir que hablo todos los días pero una vez a la semana hablo y desde luego hablamos y como le he dicho

y desde luego tanto por nuestra parte el posicionamiento es muy claro se ha dicho multitud de veces en relación a este tipo de actos es decir tenemos una condena absoluta

en el caso de la universidad también otra cuestión es que como puede darse el caso que hay casos que se nos hacen incontrolables lo digo a ellos

porque todo el día lo vemos pero desde luego nuestro posicionamiento de este gobierno y el de la universidad es claro ante este tipo de actos se lo he comentado al principio y se lo repito
es decir se deniegan este tipo de acciones es decir se deniegan eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa

compañeros y compañeras parlamentarias la verdad señor consejero de salud cuando le he visto entrar me ha dado el corazón un brinco porque digo pues si no llega el consejero pues no hablo yo tampoco

vamos a abordar muy brevemente porque vamos a tener tiempo en la próxima moción que va a dar lugar a esta interpelación la situación de la atención primaria

y unas pinceladas porque el departamento de salud ha sacado un documento importante por fin que se llama documento base estrategia para la atención primaria en euskadi lo esperábamos hace ocho años pero bueno ha salido hoy

está habiendo paros de médicos de familia ayer fue el día mundial de la atención primaria

un sistema de salud cualquiera que sea este con una atención primaria fuerte significa mejores resultados de salud en la población

significa más equidad más justicia significa mejor accesibilidad y significa mejor sostenibilidad para el conjunto del sistema de salud

hablar de autonomía hablar de autogobierno profundizar en nuestras competencias gestionar nuestros recursos es hacer política vasca es también hablar de la atención primaria de salud y cómo la mejoramos entre todos el exconsejero

apenas hizo nada en este campo el

en este campo en su anterior legislatura hizo muy poco en este campo señor consejero y han sacado este documento

muy oportuno tarde pero está en la misma línea de que

sindicatos y colectivos están dando la importancia que necesita la atención primaria de salud en los sistemas de salud para modificar las hegemonías estamos hablando hasta que el médico de familia tenga capacidad de orientar al paciente al especialista que mejor trabaje

así lo tomamos no queremos más que darle la enhorabuena

y eso que la población vasca en más de un ochenta por ciento está satisfecha con lo que mejor funciona del sistema de salud vasco

han sacado un documento el pasado noviembre que titulan documento de reflexión y propuestas para el fortalecimiento de la atención primaria en euskadi lehen

que contiene varias líneas estratégicas para fortalecer la atención primaria

y varios institutos insisto en el tema han sacado documentos sobre el tema entre ellos

de investigación y de formación de cuadros el documento que ha sacado el departamento de salud

es un documento muy completo el problema es que hay pocos datos apenas hay datos cuántos médicos de familia hay mil trescientos ochenta y cinco

cuántos médicos de familia en los pac en los puntos de atención continuada doscientos

no hay más datos pocos datos en el documento un asunto que lo debilita pocas fechas en el documento yo creo que ninguna porque detrás de formación del consejo

en trámite en proceso haciéndose ninguna apenas y no hay ningún presupuesto esto son debilidades de lo que puede ser un buen documento de debate en manos de agentes sociales en manos de agentes ciudadanos en manos de colectivos profesionales en manos de nuestros médicos

hablan de la sobrecarga del trabajo hablan del cansancio del trabajo

y hablan del envejecimiento un asunto grave que sabe el señor consejero como saben el señor consejero de la rioja de navarra de cantabria o el de extremadura que intervino en el congreso de los diputados recientemente

con la importancia que nos parece en este documento base que vamos a tener oportunidad de hablar hoy y de hablar en los próximos días uno es el tema de la autonomía de gestión que reivindica los profesionales de atención primaria autonomía inclusive económica de los centros de salud

y su propia gestión son adecuados y suficientes los profesionales existentes hoy en la red inclusive

vacaciones congresos ausencias de baja etcétera la nueva oferta pública de empleo de dos mil dieciocho contemplan las plazas de reposición por jubilaciones en profesionales de enfermería

y pediatría las políticas de incentivos para trabajar en atención primaria son las adecuadas es que no va ningún pediatra a primaria como va a ir de dos a ocho si en el hospital tienen de

la gestión del personal no es lo mismo que la administración de las personas

que le dan fortaleza que le dan personalidad se contemplan planes específicos en el documento base

tales como la incentivación en la formación de los equipos de trabajo la desburocratización de los de atención que sí se aborda el trabajo a domicilio y su potenciación que sí se aborda

que se abordan a medias el impulso de la atención domiciliaria y de calidad

etcétera etcétera la orientación comunitaria de las actividades en los centros de salud

el congreso internacional de promoción de salud que planteó la urgencia

una financiación adecuada no hay ninguna información sobre el tema de las funciones que tienen

estamos hablando de un contexto de sostenibilidad del sistema un quince por ciento

no es suficiente en nuestra opinión ya plantea el documento base para discutir e introducir la contabilidad analítica en los procesos de análisis de nuestras cuentas en los centros de salud que las osi las

parece que está disminuyendo porcentualmente tanto los gastos referidos a inversiones ajustes de plantillas

sería un veinticinco por ciento del total del presupuesto

la calidad nunca es un accidente siempre es el resultado de un esfuerzo de inteligencia

hace falta liderazgo como en una buena trainera remeros de calidad solamente una misión creíble una gestión coherente también en la microgestión puede

desmotivado es la microgestión cómo se hacen las cosas día a día y cómo se establecen las relaciones entre los profesionales con los y las pacientes

es otra preocupación abordar seriamente acerca del uso inadecuado de las estructuras sanitarias derrochamos recursos con intervenciones quirúrgicas excesivas

con ingresos inadecuados en unidades de intensivos más de los que parece

con hospitalizaciones potencialmente evitables y con un uso exagerado en ocasiones también del consumo de servicios de atención primaria

a la fragilidad y a la cronicidad de muchos de nuestros pacientes

tenemos pues una tarea fundamental en el marco del debate que nos propone el departamento de salud que es eliminar las tres b y con estos acabo

jabe gara señor uria le podía haber cedido yo un poco del tiempo porque veo que el tema

la pasión por la atención primaria sí me gustaría puntualizar el que ni ayer ni hoy ha habido ningún paro en ningún centro de atención primaria lo que ha habido ha sido concentraciones de quince minutos

laboral ordinaria que no han afectado a más de un tercio del total de centros de salud y consultorios

a nivel del conjunto del estado como usted conoce bien

la atención primaria ha jugado un papel fundamental en el sistema sanitario de euskadi

una atención sanitaria de calidad somos plenamente conscientes de ello y es justo destacar y reconocer públicamente el trabajo desarrollado

y en particular por las y los profesionales que trabajan en atención primaria en euskadi podemos decir que siempre hemos tenido un modelo de atención primaria valorado y respaldado por la sociedad vasca al igual que el modelo de salud mental comunitario

residen en una enorme accesibilidad disponemos de ciento treinta y cuatro centros de salud y ciento cincuenta y uno consultorios repartidos en los tres territorios de forma que podemos afirmar con orgullo que todas las personas que viven en euskadi tienen cerca un centro

unos profesionales cualificados especialistas en la salud global de las personas capaces de resolver directamente la mayor parte de sus problemas de salud además es muy importante reseñar que en atención primaria la problemática y el trabajo no es solo

tenemos matronas y tenemos otro personal de apoyo todos ellos imprescindibles segundo punto importante para nosotros

la continuidad asistencial que ofrecen los equipos de atención primaria toda la vida de las personas son los profesionales sanitarios de referencia desde el nacimiento

y los únicos que pueden atender a las personas además de los servicios de urgencia domiciliarias

un aspecto que con nuestra pirámide poblacional va a ser cada vez más importante y por supuesto la universalidad la atención primaria es el nivel donde la universidad se manifiesta en toda su extensión en mi opinión contamos por tanto con un buen modelo que ha permitido guiar a nuestro sistema de salud a la consecución de buenos resultados equitativa y sostenible somos también conscientes de los cambios de nuestra sociedad y la velocidad a la que se producen conocemos por tanto que debemos seguir apostando

en este caso el modelo de atención primaria a los nuevos retos sociológicos y epidemiológicos en los que la sociedad vasca está inmersa y la atención primaria y las necesidades de las personas en el ámbito comunitario han cambiado y han cambiado desde la lejana conferencia de la organización mundial de la salud

que de la misma hizo nuestro sistema de salud por ello estamos trabajando desde hace varios meses en una elaboración de una estrategia específica que nos permita fortalecer la atención primaria en el escenario actual y afronte los y las circunstancias específicas y nuevos retos que se nos plantean en primer lugar

y de dependencia no me voy a alargar en ello en segundo lugar

de la atención integrada para las personas los servicios de salud son

y también es fundamental nuestra relación con el ámbito social y en tercer lugar por el importante recambio generacional de profesionales que vamos a abordar en los próximos años

a todo ello debemos añadir porque también es importante reconocerlo

ha habido apoyado fundamentalmente en la tecnología la formación grado

y la investigación lo que ha conllevado un sentimiento de pérdida de valor en la atención primaria situación como usted ha reconocido no específica de euskadi

y en la mayoría de los sistemas de los países avanzados especialmente aquellos de corte o sistema nacional de salud como es el nuestro hay documentos de reflexión en este momento en el national health service en australia en canadá hay también una propuesta de la unión europea

en este contexto las organizaciones profesionales y las sociedades científicas están reclamando razonablemente

pero no debemos obviar que la situación de la atención primaria en euskadi y en el resto del estado no son equiparables ni en presupuesto ni en medios ni en profesionales ni en instalaciones ni en las condiciones laborales usted conoce también perfectamente

gracias en gran medida a la apuesta de los sucesivos ejecutivos por la salud y por su sistema sanitario

tenemos mucha más estabilidad laboral que en el resto de sistemas de salud hoy en día

y el noventa y dos por ciento de la plantilla de enfermería son fijos

en ambas convocatorias el entorno profesional y laboral es más atractivo con salarios más altos y jornadas más reducidas como lo confirma

que se han apuntado a la última oferta pública de empleo en concreto en la categoría

el treinta y uno por ciento de los inscritos no residen en la comunidad cuatrocientos sesenta y dos

se han inscrito en la última oferta pública de empleo también en el número de por cupo que en osakidetza está más ajustado y por debajo de la media estatal

por paciente ronden los diez minutos cosa que no se alcanza en el resto de servicios de salud del estado por lo tanto como le decía podemos compartir algunas de las reivindicaciones realizadas pero valorando la realidad

en la estrategia para mejorar la atención primaria en euskadi siendo conscientes de la problemática

mejoras me interpela hoy por un documento de trabajo un borrador que no está cerrado y que de momento está abierto

sindicales un debate sobre el modelo de atención primaria que precisamos en el contexto actual

un documento que se ha compartido con equipos directivos con profesionales y sociedades científicas un documento que contempla la atención primaria desde la perspectiva del trabajo en equipos multidisciplinares no pensando solo en las funciones y las necesidades

abierto a la participación de las diferentes categorías profesionales y también de que desde la perspectiva de un sistema integrado así como la primaria tendrá que

los hospitales en algunas especialidades igual también es importante que participen en el debate de primaria y desde luego si queremos un buen modelo de atención primaria comunitaria como si queremos mantener un buen modelo de salud mental comunitario es indispensable contemplar

de los trabajadores y la organización de los servicios sociales y socio sanitarios con este fin hemos planteado el borrador de trabajo que se ha distribuido a los equipos de atención primaria por eso faltan datos faltan calendarios

el documento es un documento a día de hoy de trabajo eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna uria jauna zurea da hitza

y apelo a que esa participación activa de los colectivos profesionales y sociales sea una realidad solamente he intentado en esta primera intervención plantear algunos asuntos que me parecían de importancia que no parecían recogidos en el documento de base en las veintinueve páginas del documento de base son mil trescientos ochenta y cinco profesionales que hacen diez millónes de consultas

dos mil dieciséis hay malestar y desmotivación en el sector créame yo entiendo lo que usted dice entiendo que el paro haya sido mayor o menor hay malestar y desmotivación usted sabe cuántos médicos de familia se van a jubilar usted se acuerda de su primer trabajo

los que empezaron la reforma en la atención primaria en mil novecientos ochenta y cinco se van a jubilar todos acuérdense que la

la ley general de sanidad en abril del ochenta y seis pero

fueron los primeros centros de salud la primera generación de médicos de familia y de médicas de familia la primera generación de enfermeras comunitarias

ochenta y cinco uno empieza a trabajar veintiocho o veintinueve años no señor consejero más treinta

se van a jubilar cuántos se van a jubilar

cuántos de esos cuatrocientos sesenta y uno que ustedes han apuntado a la oferta pública de empleo los va a poder retener

yo entiendo que hay más problemas que discutir como por ejemplo

en atención primaria cómo la llamada estrategia de cronicidad

pare parean con los pacientes hay que hacer espacios de reflexión colectivos

no se contempla se habla de una participación de tipo general no se contempla de forma definida

decía que las tres bs con las se suele a veces asignar a la primaria hay que solventarlas hay que superarlas definitivamente

banalidad burocracia y basura consultas múltiples por problemas triviales trámites cargantes con poca racionalidad y muchos deberes

hace falta pues aprovechar bien el debate que propone el departamento y que proponen los distintos colectivos sociales yo no despreciaría el documento que sacaron en noviembre del sesenta y siete me consta que con osakidetza y con el departamento de salud ya ha habido reuniones

con un documento de veintinueve páginas que hacía algunos análisis y hacía algunas propuestas no muy profundo pero ponía

hoy son cuatrocientos veinte es un foro virtual que están debatiendo en escasamente tres meses

yo la verdad si pudiera

como usted ha mencionado en parte intentaría hacerlo porque solamente la gente se vincula a los objetivos de cambio cuando participa de su debate

intentaría que esta ope fuese un valor positivo para el sistema

más que los médicos de familia me preocupan los pediatras se han apuntado ciento setenta y nueve

de dos a ocho a un centro de salud si no está incentivado adecuadamente si no está motivado adecuadamente en su trabajo profesional

no va a ir a un hospital porque va a ser prioritario un conjunto de actividades en los centros de salud

nuestros pediatras jóvenes y vamos a ver qué opinan nuestros médicos de familia el mercado

en mi opinión este documento es un documento que puede ser

bajo el punto de vista de la incentivación de los profesionales y participan en su debate y si tienen en cuenta el conjunto de propuestas que tienen que ver con lo micro con la gestión de cada día

saber lo que decía su amigo como luego tiene una pregunta puede dedicarle quince segundos y nos lo cuenta

lo de ayer no hubo ningún paro cuántos médicos de familia se van a jubilar pues tenemos una previsión pero créame

trabajar hasta los sesenta y ocho años y en función del tiempo de su vida laboral y le voy a poner un ejemplo que a usted y yo nos sonará usted mismo

unos meses al año y sin embargo ha vuelto a coger usted por cuatro años una jornada completa entonces no es fácil cuántos vamos a tener y cuántos no el departamento de salud

y para nosotros es un desafío un desafío que es global la situación que se da respecto a la atención primaria

no es propia nuestra y vamos a intentar buscar una solución que la está buscando el reino unido que la están buscando la mayor parte de los países

ya al inicio de la presente legislatura cuando presentamos las líneas estratégicas del departamento anunciamos que potenciar la atención primaria era un objetivo importante para el departamento de salud para nosotros incorporar el mayor numero de colectivos al debate es importante y cómo no también incorporar las asociaciones de pacientes

relación por la propia estructura y la atomización que tienen las asociaciones de pacientes en euskadi donde muchas veces tenemos tres asociaciones por cada una de las patologías con lo cual nos cuesta pero ese es uno de los objetivos para dar una respuesta adecuada a las nuevas necesidades de la sociedad vasca en materia de salud es para lo que hemos hecho

de debate el documento dado que usted parece que dispone de él le voy a adelantar que contempla siete líneas de actuación la primera que pretende optimizar los aspectos de organización y gestión de los equipos de atención primaria la segunda que tiene el objetivo de afianzar un modelo de trabajo en equipo en el que a cada perfil profesional

la tercera línea que busca revalorizar la función y el papel de la atención primaria en nuestra sociedad la cuarta línea que pretende mejorar el atractivo

para los pediatras y para el resto de colectivos y contempla hacer más

pero yo no voy a compartir el que los pediatras no pueden atender a los niños por la tarde

cualquier profesional de osakidetza en función de cómo este organizada la actividad

para eso nos dedica el gobierno un tercio de su presupuesto que pagan los ciudadanos

para conciliar la vida familiar y laboral y luego vamos a tener colectivo que esgrimiendo

exigen trabajar solo por la mañana la sexta línea tiene que ver con la pediatría en atención primaria

en la comunidad por pediatras y por enfermeras de pediatría y la

está relacionada con la normalización lingüística y la igualdad de género

todavía lo es en atención primaria creemos que es fundamental por ser

de actuación a donde atendemos a las personas estas son de manera resumida las líneas de actuación planteadas con el objetivo de hacer una atención primaria fuerte y capaz de conducir

asistencial en definitiva señor uria en respuesta a su pregunta le diré que efectivamente la estrategia que quiere estar

reforzar el papel de la atención primaria somos conscientes de que tenemos que hacerlo con los diferentes colectivos y agentes implicados

implicar a todo el mundo en la solución y además somos conscientes de que no está fácil porque es el mismo problema que tiene en este momento los servicios de salud de la mayor parte de países de nuestro entorno

y esfuerzo por parte de todos lo vamos a conseguir como lo hemos hecho en otras ocasiones eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako

compañeros y compañeras parlamentarias lo que mi amigo dice es entérate de lo que tus pacientes quieren y o necesitan

hace mejor o pueden aprender y esto favorecen que se discutan estructuras que reflexionen colectivamente

si no hubiese habido tres elementos que me motivaron a ello uno

y de bildu y de otros grupos políticos en el ayuntamiento de durango planteó una moción

veinticuatro horas de pediatras en durangoaldea

alcaldesa de durango que hacer un voto de calidad para no perder la votación

la plataforma ciudadana estaba a día de ayer en

menores en durango prácticamente el cien por ciento de las amas de los aitas

que tiene hijos menores están preocupados pero por qué están preocupados pues porque tiene cuatro pediatras hasta las tres y porque tienen un pediatra hasta las cinco quién los de durango amorebieta iurreta berriz mañaria

el que estaba leyendo estas cosas y

decía en público es sangrante la falta de pediatras

pegándose no puede ser hombre blanca roncal laura garrido

han pedido siempre comparecencias por el tema de la falta de pediatras

vaya lio por qué no lo ha resuelto gabi inclán le ha tocado

y además se va a jubilar esther la pediatra del centro de salud de matiena y se va a jubilar kike del centro de salud de galdakao

del centro de salud de iurreta y se van a jubilar ramón de olaguibel y otras dos pediatras de gasteiz es que es así usted tiene que tener la pirámide de población de nuestros profesionales

le ha tocado tiene que resolverlo tiene más de ocho medidas en el documento base que usted ha mencionado y que yo ya me lo he leído y me lo voy a volver a leer

tiene que explicar a la gente un plan director de pediatría sin miedo tiene que explicar

no está solucionado yo creo que

que las pirámides de población de la gente de la costa cambia radicalmente y de ser poblaciones envejecidas son poblaciones llenas de niños y de niñas desde junio ya

la gente de lekeitio sabe que tiene que ir a cruces de durango a amorebieta

el lehendakari no sé si tiene eskerrik asko uria jauna

dispone de un modelo de pediatría en atención primaria conocido consolidado

un modelo que garantiza de forma uniforme y con equidad la atención ordinaria y urgente a niños y niñas complementando la atención de los equipos de atención primaria con la de los pac

en lekeitio en karrantza en laudio en donostia en gasteiz y en bilbao y usted lo conoce

disponen de una atención sanitaria pediátrica de calidad durante las veinticuatro horas del día equiparable

mejores sanitarios del país del mundo que usted elija para comparar

en equidad con el resto de la población pediátrica de euskadi yo no me atrevería a firmar poner lo que no se puede poner en el resto entre otras cosas porque probablemente

como usted conoce perfectamente bien todos los profesionales sanitarios que atienden a la población infantil pediatras médicos y médicas de los pac y personal de enfermería están perfectamente cualificados para atender a la población pediátrica y si fuera necesario realizar una derivación a la urgencia del hospital de referencia que en el caso de euskadi y con alguna honrosa excepción como pudiera ser el valle de carranza nadie está

de la urgencia del hospital de referencia eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

en el tintero señor uria recomendarle bajarse de la web el estudio pediatría en europa organización y formación publicado en la revista archives of disease in childhood por un autor reputado como es

después del análisis de la atención pediátrica en el conjunto de los países de la unión europea concluía que solo

el veinticinco por ciento de los países europeos disponen de pediatras en la atención primaria y no solo en los hospitales

entre ellos euskadi dice usted que me ha tocado a mí resolver el problema yo la verdad es que

es verdad pero creo que hay más una percepción de problema que problema real y ahí están los indicadores

infantil y entre otras cosas me va a tocar afrontar el problema no porque no lo haya resuelto el consejero bengoa o el consejero inclán o etcétera

es el mismo que había entre los años ochenta y nueve y noventa y dos y si yo no recuerdo mal

precisamente en la comarca interior por la que hoy me interpela

comparto que en aquel momento la organización pediátrica era correcta y usted debiera compartir por coherencia y responsabilidad que la de hoy es también correcta

pediatras veinticuatro horas no le veo soy muy consciente de los conocimientos que usted atesora para hacer populismo con esto eskerrik asko

señorías señor casanova me extraña un poco su pregunta porque efectivamente el jueves pasado se anunció una

e inmediatamente para el día siguiente convoqué a sindicatos y a patronales del sector para tomar la temperatura de la situación e hice una comparecencia pública en la que expresé mi posición al respecto

en radio en radio euskadi en la que volví a insistir en los mismos argumentos que había utilizado en la primera comparecencia argumentos por lo tanto públicamente y que usted en esa pregunta pues parece

esos principios eran el primero la defensa de la negociación colectiva con el mejor mecanismo para conciliar intereses entre la patronal y los representantes de los sindicatos sobre todo

la defensa también del derecho de huelga y en concreto el derecho de huelga

y más allá de la defensa de la negociación colectiva la defensa de valores clásicos del socialismo como son la defensa del principio de equidad y de trato igual a los trabajadores que trabajan o que desarrollan su actividad en el mismo sector ya sean

ya sean trabajadores que dependen de distintas empresas o ya sean trabajadores que tienen distintos contratos cosa que afecta especialmente a los jóvenes

de la no aplicación de ese principio de equidad y por fin también la defensa del valor de organizar

una cumbre que sigo considerando desde el momento en el que trabajamos para conseguirla que es una oportunidad para demostrar que donostia y euskadi son un espacio seguro y eficaz para

sí me preocupan las condiciones laborales de los trabajadores y también me preocupa la imagen del país entre otras cosas porque si no creamos riqueza no la vamos a poder repartir de manera justa por eso yo defiendo lo hice desde el principio defiendo las condiciones justas de los trabajadores y defiendo también que la cumbre mundial se realice con garantías y se realice en donostia san sebastián y en euskadi puede usted decir lo mismo

no solo por el valor intrínseco de la misma sino que eso significaría además que ha habido un acuerdo en esta cuestión y que por tanto se ha desconvocado la huelga de la única manera que se va a desconvocar o que se puede desconvocar

para los trabajadores usted mencionaba una respuesta inmediata por parte del gobierno y en la prensa también se jactaba de ello

tarde muy tarde y en segundo lugar mal han actuado rápidamente con respecto a la convocatoria de la huelga prácticamente inmediatamente

la mesa de negociación del convenio colectivo de hoteles de gipuzkoa se constituye

de dos mil diecisiete han pasado quince meses sin que su gobierno que ha saltado como un resorte ante una convocatoria de huelga haya movido un solo dedo

han estado quince meses sin hacer absolutamente nada por eso les décimos que han actuado tarde y han actuado mal

no solo los titulares pero su respuesta lo que ha dado pie es a este tipo de titulares a que la prensa de este país se inunde de titulares en los que se relaciona la huelga con el desprestigio de la imagen de este país y eso es inaceptable no era su intención pero esto es lo que han conseguido y mire los trabajadores y trabajadoras tenemos pocos instrumentos para defendernos de la ofensiva neoliberal que estamos sufriendo y la huelga es uno de ellos un instrumento gracias al cual tenemos muchos de los derechos que a día de hoy tenemos y no se puede permitir que por parte de un gobierno en este caso por parte de su departamento

se ponga en tela de juicio el derecho a la huelga cada vez que hay una convocatoria que no les satisface por supuesto que se puede estar en desacuerdo con una convocatoria de huelga concreta

una huelga en unas fechas un tanto molestas para su departamento

turístico de este país es que se externalicen servicios para contratar a camareras de piso pagándolas seiscientos euros al mes por realizar unas jornadas de trabajo agotadoras ustedes han invertido el orden de las responsabilidades ustedes han puesto la pelota de querer desprestigiar a este país y al turismo de este país en manos de los trabajos y no en manos de adegi y de la federación de hostelería

de no dar pie a este tipo de situaciones de precariedad y explotación

la traslade usted ahora a una pregunta al gobierno en concreto a mi persona insisto en que lo he dicho desde el principio y le voy a citar literalmente una parte de mi intervención pública al día siguiente de la convocatoria y después de haber hablado y así se lo trasladé a ellos también con sindicatos y con patronales en la medida en que ambos actores admiten como yo la defensa de la negociación colectiva y la consecución de los mismos derechos y de las mismas condiciones laborales para todos los trabajadores de la hotelería

efectivamente en que consiguieran un acuerdo y que eso fuera la forma de evitar en esas claves trabajo porque sigo considerando que es muy importante para euskadi que

se celebre en euskadi y que mostremos una imagen de capacidad y de seriedad al mundo no solamente en términos turísticos sino también para la proyección de euskadi en un mundo global que aun siendo un país pequeño tiene que competir en ese mundo global como también

otra cumbre internacional de otro rango pero específicamente de turismo enológico para vitoria gasteiz yo

al plan estratégico de turismo comercio y consumo dos mil diecisiete dos mil veinte en este plan está incluido el plan director de comercio vasco dos mil diecisiete dos mil veinte

sintetizados en la idea de más empleo reducción del desempleo por debajo del diez por ciento más riqueza

mejor distribución de esta riqueza reducción de un veinte por ciento de la tasa de pobreza el veinte de febrero comparecieron las asociaciones de comerciantes en esta cámara organizaciones comerciales gerencias del sector comercial de las tres capitales

nos contaron que tuvieron entrevista individual con la empresa redactora del plan taller de trabajo con el departamento de comercio pero desconocían que el plan estaba terminado

los ejes del plan y las líneas de actuación después de cuatro meses del visto bueno de este plan

para cuándo piensa presentarlo a los principales actores del plan señor consejero

gracias señora presidenta señorías señora lópez de ocariz se empeña usted en una idea que ya le vi que la repitió una y otra vez incluso la repitió por dos veces a cada uno de sus interlocutores porque confundía la presentación con el momento de formulación de la pregunta se empeña usted decía

sugerir la no participación del sector en el desarrollo en la elaboración del plan sí la vi preguntarlo varias veces y eso a pesar del revolcón que recibió precisamente en esa comisión de comercio del día veinte de febrero en la que una y otra vez usted decía pero de verdad que usted no ha participado y una y otra vez le respondían que efectivamente sí

la elaboración del plan estratégico que era

en diciembre del año pasado un plan que incluye en ese plan estratégico que incluye el plan director de comercio

en la que participó el sector en la que participaron los agentes asociativos del sector y que se canalizó a través de una serie de medidas que fueron las entrevistas individuales o personalizadas el dispositivo de participación on line y telefónico con un teléfono novecientos para la recogida de aportaciones y opiniones

dinámicas de reflexión colectivas estructuradas en torno a diferentes grupos de trabajo las entrevistas en profundidad se desarrollaron con actores relevantes responsables de las federaciones de comercio representantes de las asociaciones zonales las gerencias de las plataformas urbanas

de comercio las cámaras de comercio empresas relevantes y entidades bancarias el espacio web de participación

las opiniones y las aportaciones de comerciantes de agentes institucionales como la red

el tejido asociativo del sector asociaciones de consumidores organizaciones sindicales

se estructuraron a nivel por una parte territorial y por otra sectorial sobre la situación y las alternativas de futuro del sector y una vez realizada esa reflexión en cada uno de esos grupos se sumaron se sintetizaron

de forma cruzada para dar a conocer al sector y para la puesta en común y discusión de esas conclusiones alcanzadas por lo tanto decía y como no podía ser de otra manera se ha contado con el sector se han tenido en cuenta sus aportaciones y el sector ha estado informado en todo momento de la elaboración del plan muchas gracias

no le he dicho que no participaron le he dicho lo que textualmente está transcrito de la comisión

reunión de comerciantes puesto en común eso es lo que está transcrito

y le he preguntado que no me ha contestado para cuándo piensa presentar el plan definitivo que no lo conocen

han hecho ustedes correcciones han tenido en cuenta mire señor consejero

pierde ventas durante el primer trimestre de dos mil dieciocho con respecto al mismo periodo del año anterior el presidente de cecobi decía la situación empieza a ser preocupante

tampoco en la rebajas de primavera están suponiendo un impulso al sector por lo tanto señor consejero

porque el eslogan del plan dice nuevas políticas para nuevos tiempos

los agentes que las tienen que aplicar no las conocen no saben cuál es pero eso sí también lo dijeron en la comisión eso no le han pasado lo que

que no lo conocían que se había aprobado definitivamente que no sabían que estaba el texto

oiga no lea algunas cosas y mal retorcidas dice el texto del plan

del parque comercial y dificultades renovar el sector la mejora competitiva

de un plan que tienen ustedes cuatro meses en el cajón y que no lo conoce el sector del comercio no lo conocen

yo creo que es hora de que lo presenten de que acuerden con ellos

no les convocan para hablar del plan director del comercio eskerrik asko lópez de ocariz anderea amaitzeko retortillo jauna zurea da hitza

señora lópez de ocariz ve como se empeña en que el sector no participa reduce la participación

a lo que usted dice a partir de esa comisión y yo le he hablado de que había muchos más actores presentes del sector en esa elaboración del plan en cualquier caso respecto a la pregunta concreta sobre qué está encerrado en un cajón el plan es para orientar y articular la política del gobierno y obviamente no está escondido en un cajón ese plan la comunicación por la que me pregunta ha sido está siendo y seguirá siendo realizada por los cauces habituales tanto a la viceconsejera de comercio como el director de comercio han tenido más de una treintena de reuniones desde la aprobación del plan hasta ahora en esas reuniones cuando se suscitan preguntas sobre los contenidos del plan sobre aspectos o sobre el conjunto del plan esas preguntas son atendidas señora

además un acto público está pendiente por pura cortesía parlamentaria a que se sustancie

en comisión que he solicitado de ese plan y por fin el plan director completo está disponible desde que se aprobó en la página web del
departamento cauces habituales de comunicación entre el departamento y el sector al que nos debemos muchas gracias eskerrik asko